buenos días egun on presidenta gracias señorías buenos días de nuevo bien

relación con esta iniciativa un acuerdo al que ha llegado este grupo con

grupos que apoyan al gobierno con el grupo nacionalista vasco y grupo

planteamos esta iniciativa esta proposición no de ley para su debate urgente en pleno

y medianas empresas empresas individuales y profesionales autónomos para el año dos mil veinte queríamos dar más garantías queríamos que estas ayudas este programa se extendiese pues debido pues a las condiciones en las que vivimos segunda oleada de la pandemia empresas con problemas empresarios y autónomos pues con problemas en ese sentido y lo solicitábamos

pudiesemos aprobar una iniciativa de estas características antes

entendíamos y recordamos que el gobierno vasco mediante decreto cincuenta barra dos mil veinte

aprobó el programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas personas empresarias individuales profesionales autónomos para el año dos mil veinte para responder al impacto

dicho programa de apoyo financiero fue dotado entonces con un máximo de quinientos millónes de euros

y tenía como objetivo atender las necesidades de liquidez y financiación de circulante de seis meses

y se fijó como sociedad colaboradora de garantía recíproca a elkargi estableciéndose igualmente las entidades financieras colaboradoras

que las proyecciones se habían quedado cortas ya que la demanda de financiación a través de las entidades colaboradoras que estaban haciendo pymes autónomos personas emprendedoras en los

y como consecuencia de dicha demanda mediante decreto sesenta y siete barra dos mil veinte hubo que entre otras cosas ampliar el volumen de financiación de quinientos a mil millónes de euros incrementar de cien a ciento cincuenta el importe

bien en la situación actual y habiendo padecido o estando padeciendo la segunda ola de la pandemia con el estado de alarma

con las limitaciones en la actividad acordadas por el gobierno vasco hoy está el día de enterarnos de cuáles son las nuevas restricciones o la nueva situación que afectan directamente a muchas personas pero sobre todo a muchos sectores y también a directamente a muchos sectores de actividad empresarial

a muchos a otros muchos con importe con caída de los pedidos muy importante caída de los pedidos y la facturación en muchos de esos casos con un impacto también importante de esta crisis en el tejido productivo

se va a alargar entendemos que se va a alargar y que profundizar en el tiempo más de lo previsto pues entendíamos que se hacía necesario adoptar una iniciativa de estas características

y llevar a cabo las modificaciones de esos decretos o aprobar otros nuevos decretos en las condiciones de los prestamos

a través de ese programa para flexibilizarlas para evitar que se produzcan situaciones complicadas irreversibles en la medida de lo posible para esas pymes para esos autónomos para esas personas empresarias para esos emprendedores así se hace necesario entre otras cosas

entre otras cosas modificar las bases para ampliar los meses para los cuales se puede pedir financiación así como también valorar la solicitud no solo

estructurales sino también de inversión con las condiciones que se estimen convenientes siendo necesario también ampliar los periodos de carencia y los plazos de devolución de los prestamos entre otras cuestiones tal y como se ha hecho ya también en el ámbito de españa en el ámbito nacional con los prestamos avalados por el ico por el instituto de crédito oficial que entre otras modificaciones pues lo que solicitábamos y lo que pedimos

de carencia de uno a dos años y el plazo de devolución de cinco a ocho años

ayudar al gobierno también como parlamento y como tejido social que somos y que pretendemos que también que lo sea y que arrastre las posibilidades económicas

parece que está dispuesto y efectivamente eso saludamos esa actitud se mueva y haga lo

una proposición no de ley clara para modificar las bases y condiciones del programa de apoyo financiero a pymes y autónomos con motivo de la covid diecinueve prestamos avalados por el a fin de dotar de esa mayor flexibilidad al tejido productivo ya contemplábamos una serie

en la transacción la ampliación del periodo de concesión más allá del dos mil veinte pues cuestiones que tengan que ver con los gastos y con la financiación la ampliación del periodo de carencia de los prestamos a dos años lo que tenga que ver con la ampliación del reintegro de los prestamos cuando menos a ocho años como pasaba con

a la financiación a la prórroga al seguir desarrollando este tipo de programas y

bueno entendíamos y también lo ha entendido la mayoría de además todos los grupos los que han enmendado que era necesario

a los emprendedores hay que preservar su actividad desde luego con todas nuestras fuerzas posibles y con todas las fuerzas

aplicar y este es el momento además para hacerlo no hay que ayudar a mantenerlas en funcionamiento y con capacidad social con capacidad de contratación con capacidad de inversión hay que mantenerlas para cuando se pase la crisis o sea ese es el elemento fundamental y esta iniciativa aprobarla pues qué es lo que aportará pues esta iniciativa dará confianza

instrumentos habrá que analizarlo como se ha hecho en dos mil veinte

flexibilidad también y por instrumentos desde luego eficaces y que satisfagan las necesidades y habrá que analizar

y funcionar en esas claves presentamos esta iniciativa coincide con la inquietud que nos han trasladado empresarios pequeños y medianos empresarios autónomos personas emprendedoras sus asociaciones esta iniciativa y fue coincidente con las además recientemente con las declaraciones de este mismo lunes en un periódico vasco

medio guipuzcoano el presidente dijo además era muy claro y muy gráfico el señor

se le preguntaba está negociando elkargi con sus reavalistas celsa y gobierno vasco para

se estaba hablando y decía principalmente con celsa

compañía española de reafianzamiento y decía él que administra fondos europeos del fdi dependemos mucho de europa y eso es verdad

las mismas condiciones anunciadas recientemente por el ico dos años de carencia y ocho de plazo tendría que ser así tenemos tiempo me gustaría que en enero estuviese resuelto bueno pues nosotros hemos venido con nuestra iniciativa a aportar a crear las condiciones para que en enero pueda estar resuelto no y además hacerlo instando al gobierno vasco el señor presidente de elkargi hablaba que en este momento están más en contacto con celsa pero está claro que el elemento fundamental son los dos es celsa y es el gobierno vasco

y la oportunidad del acuerdo alcanzado con otros grupos que se refleja en la enmienda de transacción queremos decir que hemos alcanzado un acuerdo en relación con esta cuestión

para el próximo ejercicio dos mil veintiuno un nuevo programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas a personas empresarias individuales profesionales autónomos que establezca nuevas condiciones de acceso a los prestamos ampliando entre otros extremos el periodo de carencia

de uno a dos años así como el plazo para su reintegro de cinco a ocho años que cree una línea específica de apoyo financiero a los sectores más castigados

elemento fundamental que posibilite el acceso a esas mismas condiciones a dos años a ocho años a los beneficiarios del programa vigente este año

acuerdo importante que va a hacer que el gobierno tenga que programar reprogramar modificar actualizar es decir y

pymes a los autónomos a las personas emprendedoras

esas cuestiones yo tengo que agradecer también la enmienda de totalidad del grupo eh bildu

de las peticiones tengo que decir también que bueno el primer punto forma parte de la actividad

es una solicitud de información documentada mi grupo la está tramitando también a los efectos de actualizar

del trabajo de la diputación permanente se dieron datos

solicitar pero desde luego es que es constructivo lo que de la misma manera que el extender

aplique cantidades y describa cantidades reales y realistas en relación con lo que está pasando

evitado el poner una cantidad porque más es el acuerdo de ampliar y de asegurar las condiciones y también ampliarlo al dos mil veintiuno ese es elemento fundamental pero bueno le invito al señor

a los beneficiarios del programa vigente en el año dos mil veinte quiero entender que lo que se plantea es que las condiciones de ese programa dos mil veintiuno se aplicarán con carácter retroactivo a las personas que ya están en posesión o están disfrutando de uno de estos créditos quiero entender así y que no

está claro que no es así pero que no signifique que las personas que tienen un crédito podrán acceder a un nuevo crédito de este programa en esas condiciones

propone es la retroactividad en la flexibilidad de las condiciones

transaccional contará con nuestro voto favorable eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

la necesidad de dotar de herramientas a nuestras empresas especialmente a las medianas y pequeñas a los autónomos y emprendedores a fin de garantizar que el tejido productivo en euskadi sufra de la menor manera posible los efectos de esta crisis sanitaria que se está

de manera muy severa quizá no se trate de innovar sino precisamente de poner a punto los instrumentos de los que a nuestras empresas mejorándolos y adaptándolos a esta nueva realidad en función también de la evolución de la pandemia y de la situación que estamos viviendo ante una situación excepcional se requiere también de medidas excepcionales medidas que desde diferentes ámbitos han trabajado en este gobierno a fin de dotar herramientas útiles de acuerdo a una situación hasta la fecha

en unas circunstancias en las que los mercados entran en pánico el consumo y la demanda se comportan de manera tan irregular y el futuro es tan difícilmente predecible

desde los diferentes sectores sectores que por otra parte

diferentes entre unos y otros y ahí en las herramientas comunes es donde podemos encontrar soluciones en base a lo ya construido y en base también

de las medidas aprobadas por el gobierno vasco hace unos meses desde luego coincidimos con la propuesta original en la necesidad de buscar e incrementar nuevas líneas de financiación para nuestras empresas si me lo permiten

quisimos concretar lo que en origen consideramos que es una solicitud

había posibilidad de concretarlo y en conversaciones con el gobierno así lo hemos querido hacer y eso ha derivado también en ese acuerdo transaccional que reitero considero que es de gran relevancia creemos que es muy necesario que durante el próximo ejercicio en el año dos mil veintiuno se apruebe un nuevo programa

un programa que permita dar liquidez y a su vez viabilidad y futuro tanto a las empresas como a los proyectos concretos que quieran desarrollar un programa que establezca nuevas condiciones de acceso a los prestamos ampliando entre otros extremos el periodo de carencia de los mismos de uno a dos años una medida que sin duda

financieramente y da un margen prudente para comenzar a amortizar las cantidades solicitadas

de cinco a ocho años un margen temporal que casi duplica el actual como también consideramos necesaria de una línea específica de apoyo financiero a determinados sectores los más castigados a causa de esta pandemia centrándonos así en las empresas y proyectos

que más necesitan de este tipo de herramientas y de ayudas y que además posibilite el acceso a esas nuevas condiciones a los beneficiarios

este año dos mil veinte sin cerrar el paso a aquellos y aquellas que ya lo solicitaron dentro de los programas de financiación que ya se encuentran en marcha solicitaba el señor casanova una aclaración y al respecto tengo que decir y espero

se trata de un nuevo programa no es una prolongación del anterior por tanto lo que se ha pretendido con ese párrafo es dar posibilidad a aquellas empresas que ya se han acogido

que también puedan hacerlo en este próximo programa que se pueda poner

no se aplica con carácter retroactivo sino que siendo un nuevo programa a los que se acogieron en el anterior a poderse acoger sin cerrarles la puerta y por tanto prolongando así de esta manera la posibilidad de acogerse al mismo en definitiva de lo que se trata es de que pongamos las herramientas que están a nuestro alcance para que nuestro tejido social

superen esta situación en la que es necesaria la concurrencia de todas las administraciones y de todos y de todas espero con esto señor casanova

las dudas y desde luego al igual que lo ha hecho el señor barrio invito a los grupos políticos a que se sumen a esta iniciativa a esta

siempre ha estado acompañando y ayudando a las pequeñas y medianas empresas

podido acusar los efectos que esta situación ha estado ocasionando este virus

nadie estaba preparado y nadie sabe tampoco hasta dónde llegará esta situación hay incertidumbre sí

la certeza de que el ejecutivo vasco seguirá arropando y atendiendo las necesidades de todas las empresas en los nuevos escenarios que puedan darse el instrumento sobre el que

se ha demostrado eficaz para el objetivo que perseguía que no era otro que el de atender las tensiones de liquidez de las compañías

el fin por lo tanto era garantizar la solvencia de las empresas viables y se ha conseguido

de esta medida no es algo que lo piense esta parlamentaria que también es algo que le he oído decir al presidente de elkargi josu sánchez quien ha dicho en varias ocasiones que estos avales se han revelado

pero como señalaba antes es evidente que la crisis nos está golpeando intensamente y que será necesario

y eso es precisamente a lo que este gobierno se compromete y que desarrollaré con posterioridad primero me detengo en la iniciativa original que hoy nos ha traído el grupo popular ciudadanos

bajo la fórmula genérica de instar al gobierno vasco a modificar las bases y condiciones del programa para propiciar una mayor flexibilidad en el acceso al mismo

la iniciativa realiza varios requerimientos y leo literalmente aunque ya se han mencionado con anterioridad

la ampliación de los meses para cuyos gastos se puede solicitar financiación superando los seis actuales

la ampliación del plazo de reintegro de los prestamos cuando menos a ocho años

este programa aprobado mediante el decreto cincuenta barra dos mil veinte de treinta y uno de marzo como

tenía como objetivo instrumentar desde las instituciones públicas

de euskadi dar cobertura a los gastos fijos de estructura de las empresas

por tanto cuando décimos que debemos estar cerca de las empresas lo hacemos y este es un ejemplo más de ello

adicionales posteriores importe que parece ser suficiente

analizada la situación financiera de todos los miles de proyectos que han gestionado y la complementariedad existente con otros productos que hay en el mercado podemos decir a la vista de los datos que ha sido una fórmula exitosa en la colaboración público privada en cuanto a los destinatarios finales del programa constituido por el colectivo de pequeñas y medianas empresas

sus implicaciones en el conjunto de la actividad productiva y su menor capacidad relativa de acceso a los mercados de financiación mayorista

y gracias a este programa se ha dado acceso a la financiación a este colectivo inyectando setecientos treinta y seis millónes de euros datos a cuatro de diciembre

dando respuesta a la difícil situación por la que atraviesan las empresas de nuestro entorno a raíz de la crisis de la covid diecinueve y que ha sido clave y determinante para el mantenimiento del empleo

posibilitar que en coyunturas de crisis como la actual los proyectos empresariales tengan continuidad es parte de nuestro adn es de justicia en este punto y en este debate

por su gran trabajo y rapidez en la puesta en marcha de este fondo covid

tras habilitar la plataforma digital en cuestión de pocos días se recibieron

y que atendiendo a las urgentes necesidades de liquidez se ha contribuido al mantenimiento de más de ciento sesenta mil empleos por tanto desde aquí

a que esta fórmula impulsada por el gobierno vasco sea eficiente y eficaz logrando el cumplimiento de su objetivo con éxito ahora

para volver a financiar a las pequeñas y medianas empresas empresarios individuales y autónomos

proponemos al gobierno vasco aprobar para el próximo ejercicio dos mil veintiuno un nuevo programa de apoyo financiero

otros extremos el periodo de carencia de modo que las empresas dispongan de hasta dos años para devolver los prestamos o también alargando el plazo de vencimiento de los prestamos hasta ocho años de los actuales cinco la flexibilización de estas medidas va en línea también con lo solicitado por eh bildu en su enmienda

original de ahí nuestra transaccional en la enmienda que hemos presentado junto con el partido socialista y en la transaccional con el grupo popular ciudadanos pedimos también al gobierno vasco que cree una línea específica de apoyo financiero a los sectores más castigados por la pandemia y que posibilite el acceso a esas nuevas condiciones a los beneficios del programa vigente este año dos mil veinte

a aquellos que hayan solicitado esta ayuda en dos mil veinte

en resumen planteamos al gobierno vasco la aprobación de un nuevo programa financiero para el ejercicio dos mil veintiuno ampliando los periodos de carencia y amortización para propiciar una mayor flexibilidad en el acceso al mismo y creando una línea específica de apoyo financiero a los sectores más castigados por la pandemia

es posible que muchas empresas y personas autónomas tengan mayores dificultades para responder a sus compromisos de pago en los plazos inicialmente previstos por eso también es importante

por último agradecer a todos los partidos que vayan a apoyar nuestra enmienda eh bilduren jarrera ere eskertzekoa y también con quienes hemos pedido transar particularmente

y clave para sostener a nuestros empresarios pymes y autónomos tan relevante en nuestro tejido empresarial beste barik eskerrik asko

desde vox no abundaremos demasiado en lo ya sabido y en lo que tantas veces hemos comentado aquí a lo largo de estos últimos meses

la actualidad política vive pegada a esta circunstancia y es normal una caída de los datos macroeconómicos como la vivida en este año dos mil veinte que no se han dado nunca

cierto es como decía la representante de eaj pnv que se han aprobado ayudas y prestamos para pymes y autónomos pero sí que pediríamos desde vox al gobierno que no pusiera tan difícil el acceso a ellas

que no tiene capacidad para todo lo que es el papeleo que se le solicita por lo tanto decir que la iniciativa que trae hoy con carácter de urgencia el partido

y lo es porque debemos de ayudar por todos los canales que sean necesarios ayudar

también es flexibilizar extender los plazos y acotar la realidad del programa a la incertidumbre de esta crisis que nos ha azotado con dos olas pero que efectivamente puede traer muchas más por lo cual consideramos que aunque todas las ayudas son pocas todas se agradecen y todas son buenas

lo que tenemos claro es que si todos apoyamos estas pequeñas iniciativas y nos ponemos de acuerdo en beneficio de nuestra sociedad

por todo ello hoy aprobaremos la iniciativa que han traído a la cámara eskerrik asko eskerrik asko martínez andrea

a la transaccional del gobierno y el partido popular o de los partidos que sostienen

pero sí que nos gustaría hacer una reflexión en torno a este instrumento y a las debilidades que desde nuestro grupo parlamentario percibimos que tienen estos instrumentos crediticios en los que se asume el riesgo por parte de la administración

por serias dificultades financieras pues acuden a estos sistemas de crédito pudiendo llegar a firmar lo que sea y

que puedan establecer las entidades financieras pues

si al fin y al cabo el riesgo lo asume la administración y en este sentido

en la coyuntura actual que vivimos y escuchando a sectores muy concretos que lo están pasando francamente mal podemos concluir que lo que se solicita y

de financiación asumiendo deuda o incrementando sus ratios de deuda sino mecanismos que permitan la adecuación a las nuevas circunstancias

público ya sea a modo de subvenciones directas o intervención también directa de la administración participando en las propias empresas

queremos rescatar tejido empresarial el interés público estaría mejor enfocado como decía

meditado si por el contrario queremos rescatar a empresas las subvenciones son el mecanismo que permitiría cubrir los costes que las empresas han tenido que soportar fruto de las

con deuda cuando no tienen ingresos o pueden llegar a no tenerlos es aumentar rápidamente las probabilidades

de crédito pero ya sabemos que uno de los elementos

a la hora de poner en marcha este tipo de instrumentos de financiación a las empresas con aval de las administraciones es básicamente el principio del equilibrio presupuestario que prima sobre cualquier otra

como decía los créditos avalados desde la administración pública no son en nuestra opinión el instrumento prioritario ni

a las empresas ni a la ciudadanía en su conjunto de la situación de crisis en la que se encuentra en términos económicos

creemos que sí que animará al sector bancario a formalizar o a materializar créditos

el que asumirá el riesgo será la administración más deuda para las empresas riesgo mancomunado por parte la administración pública pan para hoy y hambre para mañana

que nuestra perspectiva ante los elementos que a nuestro juicio deben vertebrar cualquier debate sobre la intervención o la política pública sobre nuestro tejido productivo

o debería de basarse en dos puntos muy concretos pues teniendo en cuenta la situación de contracción económica de interrupción de las cadenas de valor globales y de la contracción de la demanda interna en primer lugar creemos que se deben diseñar

el hecho de que estas ayudas de crédito se den sin hacer un análisis y una reflexión respecto a qué empresas se les da nos parece un riesgo

dichas empresas y de los mercados internacionales cuya demanda trabajan estas mismas empresas para considerar a cuáles

estos créditos avalados por parte la administración y luego por otro lado

destinados al tejido productivo ya sea para su internacionalización para la diversificación de sus productos u otras iniciativas como planes de desarrollo de proveedores

con presencia en nuestro territorio así como la institucionalidad

la combinación de estos dos elementos debe sintetizarse en planificaciones estratégicas de carácter integral a diferentes niveles administrativos y escalas territoriales desde elkarrekin podemos ezker anitza creemos que los avales crediticios

no la única y no necesariamente como decía la prioritaria para abordar procesos de adecuación de las empresas a la actual circunstancia en cualquier caso

firmemente que estas líneas de financiación subvención o asesoramiento deben por regla general

concreta a un diagnóstico de rentabilidades o fuentes de empleo es decir hubiese sido también interesante plantear aunque entendemos que dificultaría

empresas el incorporar elementos de mantenimiento del empleo o como mínimo hacer un plan que dibujara

estos créditos con aval de la administración y por otro lado y se decía antes en la intervención por parte del señor casanova que esto también

la administración asume con gran esfuerzo la carga que supone este tipo de inversiones para mantener la inversión productiva en el país pero estas propuestas se realizan por parte de formaciones políticas que luego cuando hay que valorar reformas de la estructura impositiva pues

se oponen en rotundo a incrementar las tasas impositivas o los tipos impositivos

más altas a las personas más pudientes en este país y también al impuesto de sociedades para las grandes corporaciones y en este sentido creemos que es

con luego pretender socializar las pérdidas de las empresas

cuando en periodos de ganancias y de bonanza deberían de aportar a la administración mucho más de lo que aportan por concluir apoyaremos la transaccional básicamente porque bueno incorpora

los elementos y los requisitos que a día de hoy ya están establecidos en el ico como bien se decía en la primera intervención del portavoz del partido popular y en este sentido pareciéndonos adecuado este instrumento pero no ya digo el prioritario ni desde luego el necesario

pese a ello apoyaremos la iniciativa porque creemos que en un momento como el actual todo instrumento es útil eskerrik asko eskerrik asko

para en primer lugar agradecer desde el grupo popular ciudadanos a los portavoces parlamentarios en especial a los firmantes del acuerdo a la señora

al señor casanova por su aportación y también al señor soto por el apoyo y a la señora martínez en relación con este tema se trata como he dicho antes

de seguridad a pymes autónomos a personas emprendedoras efectivamente en la duda

el acceso a esas nuevas condiciones a los

entendemos que tiene que ser así es lo lógico en relación con el mantenimiento la sostenibilidad del programa y simplemente

que los elementos tienen que ser controlados hay que utilizar pero también hay que utilizar como este a todos los operadores y a las entidades colaboradoras quince fueron antes las que tengan que ser y que la administración desde luego controlará que el funcionamiento

de los dineros públicos de los colaboradores y de los beneficiarios el control es básico y en ese sentido pues no nos cabe duda de que será una de las condiciones exigibles

aunque no se detalle una cantidad concreta y en este tipo de casos siempre nos gusta pues saber de qué estamos hablando pero bueno vamos a dar un voto de confianza porque

contraído estos créditos y que son gente que realmente lo ha hecho porque estaba apurada y que en ese momento de apuro ha tenido

de elkarrekin podemos ezker anitza decir que bueno pues hoy nos hemos centrado en este instrumento que desde luego no es el único que existen otros

esquemas globales que están siguiendo los estados y es verdad que si hacemos la traslación a la comunidad autónoma vasca pues esos esquemas globales no se han aplicado aquí tal cual si hablamos de planes de rescate aquí no ha habido planes de rescate y si hablamos de inyección de capital

de capital si hablamos de ayudas directas ha habido pero a nuestro entender

y aquí se ha aprobado un pequeño complemento tarde mal y que todavía en muchos casos no ha llegado pero bueno da la casualidad de que estamos hablando del último de los aspectos que es el de los avales

vamos a hacer un apoyo con una serie de mejoras que van a dar oxígeno y es verdad que este instrumento no funciona igual de bien para un bar por ejemplo

daríamos prioridad o para un pequeño negocio a unas ayudas directas que no supongan una hipoteca literal pero para

tener un fácil acceso al crédito sobre todo en los momentos en los que se paró como decías la cadena de valor la cadena productiva los pagos las ventas se les acumulaban los stock pues en el momento fue un balón de oxígeno y creemos que

habría que mantener también la oferta eta azken kontu bat

en nuestra enmienda pero creo que es importante también realizar una supervisión

reparten estos créditos para tratar de evitar algo que se ha denunciado que se está produciendo en otros casos como pueden ser operaciones de refinanciación de créditos anteriores que lo que hagan sería transferir el riesgo que los bancos hubieran asumido con créditos previos

y transferir de alguna forma el riesgo asumido por el banco al sector público

se cumplan de forma estricta las condiciones de esta oferta de financiación eta gehiagorik gabe eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

creo que el llamamiento que hace unos días hizo el partido socialista de euskadi euskadiko

necesario hacerlo para conseguir amplios acuerdos y apoyos por parte de todos los grupos parlamentarios para poder superar esta crisis y a la situación venidera creo que lo que hoy hemos hecho el ejercicio de acercamiento de acuerdo que hemos hecho hoy es un buen ejemplo para que en lo sucesivo lo sigamos practicando que la mejor solución para poder superar esta crisis precisamente es eso es la mano tendida es la flexibilidad es el acercamiento de posturas es el diálogo y sobre todo es el acuerdo creo que con el acuerdo al que hemos llegado hoy estamos dando un gran ejemplo

nos hace más fuertes y sin duda alguna permite a nuestros ciudadanos y ciudadanas dotarse de herramientas para poder superar una situación que desde luego

barrio jaunari eta popular ciudadanos taldeari heldutako

seguirán con dificultades para responder a sus compromisos de pago en los plazos

y ahí debemos estar apoyándoles desde las instituciones ese ha sido

reiterar un poco lo que comentaba en mi primera intervención decir que a nosotros nos hubiese gustado estar hablando en estos momentos de otros instrumentos

subvenciones también directas a las empresas y no avales crediticios sostenidos o mancomunados con respecto

que creemos que en un momento de crisis económica como el que estamos viviendo pues bien les vendrá a los sectores económicos que lo soliciten pero decir que fundamentalmente esto más allá de a los sectores económicos que se vean beneficiados de manera directa desde luego sí

indirecta beneficia sustancialmente a la banca y al sector financiero que es

en el otorgamiento de estos créditos va a hacer uso de ellos y por otro lado también

en la medida de las posibilidades el gobierno vasco siempre tiene que sustentarlos en ciertos planes estratégicos que permitan saber y evaluar a qué empresas

herramientas para que no sean recursos públicos

terminen en saco roto y que no incentiven la generación de empleo en el país y

la oportunidad para alcanzar acuerdos en materias de este tipo que beneficiarán seguro si el gobierno vasco lo pone en marcha a sectores muy amplios de la sociedad

todos lo sabemos se sabe desde hace más de cien años que llevan cien millónes de años los hidrocarburos en la cuenca vasco cantábrica

en la que se ve perfectamente cómo desde que se empezó a perforar se han hecho hasta doscientos cincuenta y seis pozos para intentar explorar o explotar gas o petróleo vale

araba se han hecho veintinueve y en muchos de ellos ha habido

algunos momentos en los que ha habido una pequeña explotación como

o más cerca de casa las explotaciones de gas del campo castillo beraz

medio divertida porque yo pregunto claro cuando a mí me cuentan que de aquí vamos a pasar una producción multiplica por cuatro y resulta que la hemos dividido entre diez

ha habido algún problema hidrocarburos de euskadi lo que me viene a decir es que esta bajada se debe a la realización de ciertas operaciones perceptivas a la estrategia decidida por los socios y a la situación de pandemia mundial no se lo pierdan fue la situación de pandemia mundial en esta gráfica empieza aquí

había caído ya en más de un ochenta por ciento pero bueno solo les ha faltado poner la frase de bueno pues no tenemos gas porque se lo está comiendo el mapache entonces

ba armentia bigarren putzuaren bila joatea esto es un error se mire por donde se mire yo defiendo que esto es un error

técnico social presupuestario jurídico también y desde luego es un error político estar defendiendo esto en este momento climático es evidente porque toda la apuesta del dinero público tiene que ir a las energías renovables porque de verdad tenemos una urgencia atroz en este país de hacer esa transición de una manera urgente por lo cual no se entiende

de las arcas públicas dinero para dos pozos con lo cual en un momento en el que no está la cosa para hacer inversiones

una cuestión técnica también porque claro hemos hablado mucho en este parlamento sobre el carácter de esos pozos y de las técnicas y del propio yacimiento evidentemente

y si el yacimiento convencional de viura no es rentable pues ya me dirán ustedes qué vamos a sacar de un yacimiento no convencional

que puede haber en el mejor de los casos pues por tener una comparativa que sepan que los tres bcm el mejor escenario del campo de gas de la rioja sería el consumo del estado de un solo mes

que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer comparaciones también hay razones jurídicas porque

en todo caso serían nueve resulta que estos permisos se pidieron en dos mil seis y estamos en dos mil veinte de nueve de máximo

judicializado esto está en la audiencia nacional y dentro de no mucho tiempo se va a saber

estando este juicio encima no es el mejor momento no es una

en la que explica claramente que están prohibidas las actividades extractivas en el

ya sabía y lo que no entiendo es la chapuza de intentar volver a hacerlo en el mismo sitio con lo cual cometer el mismo error porque página ocho

dicen claramente que las limitaciones de uso impuestas por la actual clasificación municipal

hacen que se emita el presente documento con el objeto de trasladar la ubicación del sondeo doscientos cincuenta metros es decir hidrocarburos de euskadi sabía en el año dos mil once cuando se hizo esto que no se podía hacer y lo había reconocido el mismo no para volver a cometer el mismo error el año dos mil dieciséis

el ayuntamiento diciendo que no entonces no hay por dónde cogerlo técnicamente urbanísticamente presupuestariamente socialmente

como venimos defendiendo nosotros entendemos que hace falta un pacto serio que

para hacer la transición energética con un mínimo de consenso

desactiva cualquier tipo de posibilidad de llegar a algún acuerdo eta amaitu nahi dut

y es que las políticas del gas solamente pueden a favor del gas

de negocio un negocio que beneficia realmente a unos pocos sus defensores argumentan

hacia las energías renovables sin embargo la comunidad científica y el acuerdo de parís van

la propia agencia internacional de energía y los mercados también están confirmando que la energía solar y la eólica son ahora en este momento más baratas que el gas

de euskadi porque el gas de euskadi también contamina también contribuye al colapso climático y también es más caro el gas de euskadi que la energía solar

así que en este orden de cosas en el pleno que se debatió también en en la interpelación a la que da lugar esta moción

el proponente de esta iniciativa lo ha demostrado hoy también que el gas además de ser un veneno es una ruina

para estas aventuras en la búsqueda del gas con dinero público

lo cierto es que se han recuperado la mitad de la inversión y por lo que se ve además sigue

así pues teniendo todo esto en cuenta podemos decir que sí se está haciendo una buena labor podemos decir podemos justificar que se derroche dinero público además de empujar con ello al planeta a un colapso climático yo creo que más bien al contrario

la actuación de esta empresa va en contra del planeta contra el mercado al apostarse por una energía que es más cara que la solar y la eólica

así que en este punto de las cosas lo que todas las fuerzas políticas aquí presentes tenemos que tener claro y tenemos que dilucidar y tenemos que aclarar

interpelación también sí al partido socialista de euskadi es si estamos a favor de apostar por la innovación y las energías renovables y limpias

del modelo de explotación de gas y petróleo que nos ha llevado a una situación de emergencia climática es

no es simple pero es sencillo hoy volvemos a hablar de shesa en el parlamento y hoy

de la era de los combustibles fósiles en el país vasco en euskadi tenemos que pedir el fin de una actividad que daña la salud de las personas que deja a nuestra juventud con un planeta expuesto a sequías a inundaciones y una gran pérdida de biodiversidad

con especial hincapié en el año dos mil treinta y en euskadi la respuesta a dicha emergencia

por todo ello nuestro grupo elkarrekin podemos izquierda unida ha llegado a una transacción con el grupo proponente

a través del cual instamos al gobierno a que inicie los trámites para extinguir la actividad de shesa y para que se tomen mientras tanto las medidas para impedir cualquier inyección de dinero público

propios como de fondos de terceros también que no vaya ni un euro más para contaminar a contaminar el planeta ni un euro más contra el futuro contra la salud de las personas en nuestra enmienda además también hemos querido apoyar

a los trabajadores y a las trabajadoras de shesa porque entendemos también que el cierre

a sus trabajadores y a sus familias por eso también instamos al gobierno a buscar una salida pudiendo ser la más sencilla la reubicación en el propio ente vasco de energía en proyectos de eficiencia energética y fomento de las energías renovables y también

proponente también hemos querido hacer una mención

y a su desarrollo al fomento de las energías renovables sabemos que tenemos un pleno monográfico en el que hablaremos

y en relación con este tema creemos que también tenemos que insistir en que ese dinero

no podemos permitir que se utilice para que algunas empresas privadas centralicen la generación energética hagan negocio con ello y luego nos cobren a los consumidores mensualmente

con dinero público ese no puede ser un objetivo transformador a que aspira la unión europea

como alemania con un modelo de producción energética ampliamente

por eso hoy insistimos en que debe priorizarse proyectos de autoconsumo y de generación energética descentralizada para individuos comunidades de vecinos o

en definitiva la soberanía a la que aspiramos en elkarrekin podemos izquierda unida tiene mucho que ver pretende desde luego en relación con este tema

perpetuos y convertirlas estas personas en generadoras de su propia energía pongamos interés también en este tipo de soberanía y

a actualizarnos y a leer pues la verdad es que llega un momento en que

pero vamos intentaré despejar algunas dudas sobre todo en este momento donde parece

cierto interés por saber lo que piensa y opina el partido socialista de euskadi euskadiko ezkerra

pero en esta ocasión desde luego no sería mi intención ni dedicarme a debatir sobre su función su historia o el papel que viene jugando en esta sociedad a lo largo de sus más de treinta años de existencia por una razón

considero que todo lo que habría que decir al respecto de esos temas están dichos

le remito al diario de sesiones del pleno ordinario del veinte de diciembre de dos mil diecinueve y es que todavía no ha pasado ni un año también lo decía el señor otero desde bueno

historia etcétera etcétera de esta sociedad de hidrocarburos la posición de los socialistas vascos hoy es la misma que teníamos de aquella insisto hace la semana que viene cumple un año suscribo una a una y hago mías todas y cada una de las palabras de la señora natalia rojo

una cuestión nueva que viene a debate hoy es la que tiene que ver con la rentabilidad de esta sociedad a este respecto el pasado veintisiete de noviembre la consejera de desarrollo económico sostenibilidad y medio ambiente la señora arantza tapia tuvo la oportunidad de ofrecer una batería de datos y argumentos en relación con la rentabilidad esta sociedad otra cosa es que los datos y los argumentos

y una vez más en este sentido también me remito al diario de sesiones de dicho pleno de control haciendo mías las explicaciones aportadas por la señora consejera

puede ser un poco lo más novedoso al respecto en los últimos meses el pasado dos de diciembre conocíamos hace exactamente una semana que el consejo de gobierno de españa interesaba de las cortes generales

impulsado por la ministra de transición ecológica y reto demográfico los socialistas creemos que esta ley es la referencia que nos marcará el camino será la traslación de nuestros compromisos a un marco normativo que defina con claridad

sabemos porque sabemos que su tramitación abrirá una necesaria reflexión sobre el tipo de futuro que queremos para la sociedad de hidrocarburos de euskadi lógicamente

deberá de adaptarse como todas las demás sean públicas o privadas a las nuevas realidades normativas tanto a las españolas como a las europeas y a todo el marco internacional

sin embargo quisiera también centrar un poco la cuestión en un ámbito más general

pero bueno es lo que pasa cuando se trae un tema tan similar o parecido al de otras ocasiones

esta solo es comprensible como parte de una política energética más amplia

no es más que un engranaje que solo adquiere sentido en el contexto de la totalidad de las políticas energéticas y de cambio climático desarrolladas por el gobierno

esa es la razón por la que la enmienda presentada tanto mi grupo como por el grupo nacionalistas vascos

nos hemos marcado el desarrollo tecnológico de las tres últimas décadas ha propiciado que el aprovechamiento de energías renovables sea técnicamente viable y económicamente competitivo

basado exclusivamente en energías renovables es un mundo que no solo puede ser soñado sino que puede comenzar a planificarse pero no podemos silenciar que esta transición va a estar condicionada por la capacidad de las energías renovables

y también por la posibilidad de almacenar la energía producida dado el carácter intermitente de muchas de estas energías renovables quisiera dedicarle también algo de tiempo al segundo punto de nuestra enmienda

asumiendo las energías renovables como objetivo y recurriendo al gas natural solo como elemento de transición es decir pedimos al gobierno que tome posición ante lo que xabier garmendia ha dado en llamar el trilema de la transición eléctrica en españa porque

en la necesidad de ir alineados con los objetivos y compromisos de desarrollo sostenible acordados por la comunidad internacional es también preciso

nos hemos impuesto de cara al dos mil cincuenta porque de las tres energías primarias para generar electricidad gas natural y nuclear no vamos a poder abandonar simultáneamente las tres como mínimo será necesario una de ellas que actúe de energía de respaldo para permitir la gestión

porque hoy por hoy y en el estado actual de nuestros conocimientos técnicos una red basada en energías renovables como ya he adelantado

y por lo tanto no gestionable en tanto en cuanto no se desarrollen sistemas de almacenamiento competitivo así pues serán necesarios coger una de las energías primarias para realizar esta transición

la extinción definitiva del carbón decisión absolutamente aplaudible siendo como era la fuente de energía más contaminante de las tres por ello una vez descartado el carbón deberemos de situar el debate la búsqueda de esa energía de transición

no cabe duda y por lo menos desde la perspectiva del partido socialista que la mejor alternativa sería cerrar las centrales nucleares

de su vida regulatoria consiguiendo de esta manera abandonar este tipo de energía para el dos mil veintiocho

y nada desdeñable de eliminar cualquier riesgo de sufrir cualquier tipo de accidente nuclear lógicamente este escenario donde estamos descartando

situaría al gas como energía protagonista en ese trayecto que tenemos que recorrer como ya he dicho para poder llegar fortalecidos a los objetivos comprometidos en dos mil cincuenta

dada la infrautilización actual de centrales de gas de ciclo combinado apenas sería necesario inversiones para reforzar esta energía una vez que hayamos eliminado como hemos supuesto la energía nuclear el compromiso de los socialistas queda claramente establecido en la exposición de motivos de la ya citada ley de cambio climático y transición energética

ante una encrucijada de caminos y es el momento de tomar decisiones retrasar decisiones tal como dice la citada exposición supondría asumir más riesgos

más injustamente distribuidos pero insisto no solo se trata de definir la meta es preciso necesario y obligatorio trazar la línea que ha de unir de la manera más eficiente y sostenible posible el punto en el que nos encontramos actualmente

el camino es una parte sustancial e inevitable de esas decisiones que no podemos ni ignorar ni postergar

son muchos los elementos sobre los que todavía tendremos que seguir debatiendo en esta cámara el destino es el objetivo quizá

nadie duda de que tenemos que llegar al dos mil cincuenta cumpliendo y a ser posible superando las metas acordadas en parís esa es la meta hacia la que los socialistas pretendemos

una senda que garantice que llegaremos a una sociedad justa y próspera con una economía moderna eficiente en el uso de sus recursos competitiva y climáticamente neutra sin más no me cabe ninguna duda de que aún nos quedan

eso demuestra que este es un tema que nos preocupa a todos los grupos representados en la cámara o por lo menos a la gran mayoría de los mismos tendremos que hablar lógicamente de interconexiones

tendremos que hablar de ahorro o tendremos que hablar de eficiencia energética tendremos que hablar y adquirir todos aquellos compromisos que esperan y nos exige la ciudadanía vasca tiempo habrá por tanto
de seguir explorando caminos comunes en los que ir encontrándonos nada más muchas gracias eskerrik asko alonso jauna

el trasfondo de esta moción aquí presentada esta vez porque esta vez tiene que ver con la actuación que está llevando a cabo esta sociedad

un tanto casposo sociedad de hidrocarburos de euskadi

las perforaciones para las que se ha obtenido licencia de una manera un tanto sorprendente ya que el pgou de vitoria

es una zona protegida a la que por mucho que ustedes quieran

no van a poder explotarla y más con la nueva ley que se va a llevar a cabo de transición ecológica y en segundo que nos surgen grandes dudas con respecto a la seguridad que ofrecen estos estudios estos pozos porque el acuífero que abastece vitoria está allí no queremos contaminar

es más hoy aquí este debate viene muy bien porque en el ayuntamiento de vitoria están teniendo problemas

este tema no es nuevo en sede parlamentaria como me gusta que utilicen

cuando estaba preparando esta intervención de hoy me ha dado por buscarle una explicación

a la existencia de una sociedad anónima como esta como esta porque hoy

pero tenemos unas cuantas parecidas con diferentes objetos sin embargo parecidas

se reprodujo el modelo español aquí a pequeña escala con todas sus sociedades públicas y demás y esto venía sucediendo en muchos países

se han ido extinguiendo o privatizando ya que su función

el sentido en el que se ha legislado ha sido única y exclusivamente

en lo que a contrataciones públicas se refiere hacia un control máximo de los contratos públicos para que no hubiera espacio para el amaño la trampa o el conchaveo de quienes ostentaban el poder en las administraciones

por lo tanto la existencia de sociedades públicas aporta un halo de oscurantismo a quienes gobiernan para poder salvar la normativa tan estricta a la que se deben

de los trabajadores de las empresas públicas para ser trabajador público uno tiene que someterse a una oposición y conseguir estar entre los mejores para acceder a uno u otro propuesto de trabajo sin embargo

no tienen que pasar por una oposición o un concurso por lo tanto en el proceso de selección

lo que puede hacer un dirigente de turno es solicitar un proceso selectivo para contratar a ese individuo y el de recursos humanos de turno puede decir bien vamos a abrir un proceso para alguien con el mismo nivel académico

pero no este le va a decir no el proceso es para contratar a este sujeto

siempre hay dudas y sí señores aquí está otro de los problemas de las empresas públicas que dejan que los trabajadores sean una elección discrecional de quien

ojo que seguramente aunque no haya pasado una oposición claro que será muy buen trabajador y preparado para el puesto pero

sin haber pasado una oposición otra cosa más cuando una sociedad pública tiene en su objeto social uno igual

una competencia con el sector que genera riqueza y paga sus impuestos claro y la empresa pública que tiene pérdidas

con el erario público este también pagado con los impuestos que pagan las empresas a quienes hacemos competencia y hombre no sé

y que lo hagan ellos si pueden hacerlo incluso no sé yo si hubiesen podido los privados hacer unas perforaciones en armentia

y es un poco difícil ver la necesidad que a día de hoy tiene una actividad bien

esto pertenece más bien a sociedades en las que la democracia brilla por su ausencia

sirven para colocar amiguetes y para contratar servicios de empresas de conocidos sin embargo nos vamos a abstener

para eliminar todas las empresas públicas que no entiendo muy bien cuál es su cometido a día de hoy

ver para creer o sea esto no puede ser una prueba de fe no puede ser una prueba de fe shesa ha tenido treinta y siete años para demostrar lo que hace y lo que hace

sabemos la permeabilidad del lugar sabemos la tasa orgánica de carbono que tiene

a esto de que os empecemos a llamar los locos del gas benetan

esaten duzu zera dena esanda dagoela que está todo dicho no pero yo creo que

de este reto porque no se puede decir que se suscribe lo que dijo natalia rojo en diciembre del año pasado que yo también suscribo

porque choca porque choca porque natalia rojo lo que dijo es que por lealtad al gobierno se tragaba con un proyecto con el que no se estaba de acuerdo y arantza tapia lo que dice es que hay que impulsar el gas

así que no es compatible y usted no se puede escapar de la pregunta y la pregunta es vamos a seguir subvencionando con dinero público hidrocarburos de euskadi va a haber dinero en los presupuestos del año que viene vamos a seguir manteniendo una empresa pública cuyo único objetivo es

explotación de hidrocarburos que choca completamente con la letra y el espíritu de la ley de transición energética que ustedes están proponiendo en madrid

hablan de prohibir nuevas exploraciones y nuevas explotaciones y no solo eso no solo eso sino que ustedes hacen una apuesta clara para que desde el sector público se haga una desinversión en combustibles fósiles

metiendo enmiendas una detrás de otra en madrid para que todo eso que ustedes pretenden hacer con lo que nosotros estamos de acuerdo no se lleve adelante entonces usted se tiene que mojar usted se tiene que mojar usted tiene que decir que lo que se está proponiendo aquí seguir con una empresa pública invirtiendo en combustibles fósiles

acelerar los proyectos para que la posible aprobación en los términos que está escrita

de madrid para que no les pille con es decir para saltar esa valla que ese es el objetivo que tiene la aceleración de todo esto en este momento

que usted está de acuerdo y que suscribe lo que dice arantza tapia porque es que tanto aquí e intentando llevar adelante esos proyectos

y metiendo los torpedos de las enmiendas que están metiendo para que se siga

les tiene que generar un problema y usted no se puede escaquear de responderme

seguimos dando dinero de los presupuestos públicos del año que viene a hidrocarburos de euskadi sí o no y eso es lo que está en cuestión

la energía de respaldo para las intermitencias de las energías renovables ya se ha dicho pero bueno simplemente

deje de usar el gas de manera absoluta sino que no se emplee dinero público en fomentar la actividad de exploración y de extracción de gas

dinero público para esto ez konbentzitzeari buruz

del gobierno vasco para llevar a cabo los propósitos del acuerdo de parís es seguir derrochando dinero público

elkarrekin podemos izquierda unida asumimos como misión

donde podamos y donde estemos que esto se lleve a cabo eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea euskal sozialistak alonso jauna zurea da hitza

en diciembre había una película que se llamaba los jueves milagro y diciembre gas bien es verdad también hilando un poco con la idea

que decía exactamente lo mismo lo mismo lo mismo que se dijo hace exactamente un año así que que efectivamente bueno parece que podemos estar un poco con ese efecto de la marmota

en cuanto a la cuestión hay otra cuestión que sí que me gustaría subrayar antes de entrar un poco más

transición y transitar transición y transitar son miembros de una misma familia semántica o sea quien quiere una transición está obligado a transitar

en cuanto a la ley porque usted ha cogido los dos primeros párrafos es verdad que me lo traigo leído eh porque al final

pisando sobre seguro pero no ha oído o quizá no me he explicado yo bien puede que sea que yo hablo un poquito bajo

en el que yo he dicho que sabemos que esta ley

punto a buen entendedor pocas palabras bastan en cuanto a esta ley obviamente también he dicho que para nosotros es una ley de referencia está en tramitación sí que me hace mucha gracia porque muchas veces parece que la ley

y luego hay como una especie de ataque del resto de partidos o de grupos en el que se intenta transformar o en el que se intenta de alguna forma modificar esa ley no está el pnv

pero yo es que entiendo las leyes desde otra perspectiva y entiendo la ley como un proyecto que se presenta y se construye y se genera a través de todos los acuerdos y las aportaciones de toda la cámara

no solamente por el mero fuego aritmético que usted sabe que también es necesario sino porque eso refleja

apoyando ese proyecto seguimos apoyando la tramitación que se está realizando desde madrid y asumimos plenamente todos

que se deriven de la aprobación de la ley sea cual fuere tenemos el borrador veremos cómo termina y termine como termine nosotros asumiremos tampoco estoy diciendo nada del otro mundo decir que asumiremos la ley es una cuestión bueno le parece a usted muy obvio pero no se crea que todo el mundo lo tiene tan claro

todas y cada una de las consecuencias que se deriven de la aprobación de dicha ley y sin más

legebiltzarkideok hoy quisiera comenzar leyendo parte de un breve texto de una organización bastante activa

contra la indecente precariedad y dice lo siguiente el trabajo decente debe ser el centro de las acciones de los gobiernos para recuperar el crecimiento económico y la construcción de una nueva economía mundial que dé prioridad a las personas

precariedad que afecta a muchas personas trabajadoras con un mercado laboral caracterizado por la precariedad la temporalidad y bajos salarios hoy

de tener un empleo no logran salir de la pobreza a lo que se une la constatación a través un estudio que hemos elaborado que han elaborado

de que está normalizada la vulneración de derechos laborales sobre todo en los sectores más precarizados configurando un mercado laboral que no asegura unas condiciones

la organización revolucionaria que firma este texto se llama cáritas diocesanas mi relación con ellos como se pueden imaginar no es muy estrecha

que llevan razón nuestro grupo parlamentario décimos o venimos diciendo lo mismo

en este texto la vulneración de derechos laborales está normalizada el mercado laboral está caracterizado por la precariedad y no garantiza unas condiciones de vida dignas para la clase trabajadora por eso registrábamos en el parlamento esta

un día reivindicativo y de movilización donde diferentes organizaciones sociales sindicales políticas religiosas como han podido ver reclaman cada año en todo el mundo un trabajo digno con derechos y seguridad

con el fin de luchar por la dignidad en los empleos en los puestos de trabajo en euskadi planteamos la urgente necesidad de tomar y desarrollar medidas para hacer frente a la precariedad laboral cronificando en nuestra opinión en la población trabajadora desde hace una década y que corre el riesgo de ampliarse aun más con la excusa a raíz de la actual crisis provocada

para ello en primer lugar tenemos la obligación de evitar repetir los errores del pasado reciente y velar por que la recuperación económica no vuelva a realizarse a costa de precarizar las condiciones de trabajo porque esa fue precisamente la piedra angular sobre la que pivotó la recuperación económica

iniciada en dos mil ocho la pauperización de las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera para pagar con ello los agujeros en las cuentas del capital agujeros que los propios capitalistas habían generado conviene también recordarlo más de diez años después en la crisis de dos mil ocho junto a rescates a los bancos y recortes en los servicios públicos

fue el ataque rotundo y contundente a los derechos laborales salarios y condiciones de trabajo para ejecutarlo además se aplicaron políticas para debilitar lo máximo posible a las centrales sindicales unas políticas precedidas de auténticas campañas de desprestigio contra una figura sin la que este país

y los sindicalistas a los que quería hoy poner en valor porque los derechos existentes en el trabajo

arduamente ganados a través de la historia por la lucha de la clase trabajadora y de sus organizaciones sindicales y políticas la historia de los derechos en el trabajo

la historia de la lucha de clases sin lucha de la clase obrera organizada sin lucha de los sindicatos no habría hoy no tendríamos jornadas de ocho horas ni un mes de vacaciones pagadas ni descansos semanales no habría salario mínimo ni salarios en los convenios colectivos sin esa lucha organizada

o paternidad ni bajas laborales por enfermedad o accidente de trabajo retribuidas ni prestaciones por desempleo

no tendría paga extraordinaria ni mecanismos necesarios de seguridad en las máquinas de las fábricas ni botas de protección o indemnizaciones en caso

llena de avances pero también se trata de una historia llena de retrocesos de victorias pero también de derrotas

ha sido regalado por nadie todos y cada uno de esos derechos han sido conquistados por las y los trabajadores pero también

por la acción de quienes necesitan una clase trabajadora con los menos derechos posibles tal y como hemos podido comprobar en la última década

de empleo de calidad de empleo en condiciones dignas en definitiva es hablar por lo tanto de una pelea de una lucha constante una lucha que no se da

en ambos lados de un choque de intereses entre una clase trabajadora a la que le interesa tener buenos derechos para una vida digna y una clase capitalista para la que esos derechos

menor margen de beneficio la recuperación de derechos perdidos en la última década estaba pendiente a la llegada de la actual pandemia y la crisis provocada por el virus no puede ser la excusa para posponer u olvidarnos de esa recuperación de derechos

la recuperación de la actual crisis en nuestra opinión tiene que ser impulsada desde la conquista de mejores condiciones de trabajo y de vida para la clase trabajadora que es la mayoría de la gente de este país y que es la que crea la riqueza

para ello ya me lo han oído decir también en más de una ocasión la derogación de la reforma laboral es un primer paso que se debe dar es además un compromiso troncal recogido en el acuerdo del gobierno del estado del que formamos parte nuestra coalición que ha de cumplirse porque los acuerdos están para cumplirse

nosotros ponemos en valor el potencial que tienen los acuerdos en el marco del diálogo social pero quisiéramos que nadie se confunda no puede haber derecho de veto por parte de la patronal si no se da ese acuerdo nosotros esperamos

pero si no se da ese acuerdo alguien tendrá que elegir la coalición unidas podemos izquierda unida no somos compatibles con el mantenimiento de la reforma laboral del partido popular

se debe cambiar la legislación tal y como recoge ese acuerdo firmado

de la realidad económica social y laboral actual pero me van a permitir si algo aprendí en mis años de sindicalista

y luego en la estructura del sindicato es la fragilidad de los derechos laborales que tenemos sobre el papel siendo sindicalista

aprendí la necesidad de la acción constante y complicada para conseguir que se cumplan derechos que están reconocidos en una legislación en unos convenios en unos planes de empleo incluso

a diario a lo largo y ancho de euskadi en todo tipo de sectores y empresas

por que se cumplan los derechos existentes en la legislación y aunque una vez alcanzado un acuerdo en la iniciativa de hoy al que voy a agradecer por supuesto el esfuerzo y el trabajo que han realizado el señor aiartza y en especial el señor

un acuerdo un buen acuerdo y les agradezco mucho su esfuerzo porque creo que efectivamente es un buen acuerdo y por eso no me voy a poner especialmente crítico en el debate de hoy pero tenemos que señalar que cuando el mercado laboral está caracterizado por la precariedad cuando décimos que no garantiza unas condiciones de vida digna para la clase trabajadora y cuando décimos que la vulneración de derechos laborales está normalizada tal y como señalan

al principio la propia cáritas diocesanas pues cuando tenemos esa realidad quiere decir que las políticas no han puesto en el centro de su acción el empleo de calidad y las condiciones de trabajo

si se han puesto en el centro hasta la fecha se ha errado y no se ha hecho bien el gobierno vasco tiene que ser garante de la calidad de los empleos y tiene la capacidad si quiere de garantizar la calidad en los empleos que dependen de la administración pública impulsando el empleo público y desechando la posibilidad del empleo precario

nos hubiera gustado ir más allá en el acuerdo de hoy y seguiremos insistiendo en esta idea

la importancia del empleo público también en la lucha por el empleo digno y también que en la contratación pública el gobierno debe garantizar la calidad en los empleos

lo hemos visto por poner un ejemplo reciente en las condiciones de las plantillas de las empresas contratadas para la limpieza de educación y de la upv en la comisión de empleo y trabajo no voy a repetir lo que allí nos contaron los portavoces estaban presentes y en el ámbito de la lucha contra la precariedad laboral

la incomprensible separación en la anterior legislatura de las competencias de trabajo y empleo en departamentos diferentes pensamos que lastró la capacidad del gobierno vasco para operar en estas cuestiones pensamos que el departamento quedaba reducido a un osalan y a una inspección de trabajo cuyos recursos hemos venido diciéndolo también

son absolutamente insuficientes para garantizar que se cumple la legislación laboral y se respetan adecuadamente los derechos de las y los trabajadores en las miles de empresas existentes

de la inspección de trabajo no minusvaloramos el trabajo hecho en las campañas para la detección de los fraudes en la contratación temporal y parcial

dijimos en su día que el noventa por ciento de los contratos temporales están en fraude de ley y saludamos en su día esas campañas que destaparon buena parte de los mismos esas campañas de inspección de trabajo por lo tanto deben continuar y como queda recogido en la transacción tal y como queda recogido en la

pero se debe dotar a la inspección no solo de más recursos humanos y medios materiales sino de los recursos y medios suficientes para garantizar la máxima eficacia en la lucha contra el fraude laboral y el cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores

para el desarrollo de nuevas campañas específicas tal y como también todo esto queda reflejado en el acuerdo que hoy previsiblemente vamos a aprobar en este parlamento porque el empleo decente y me gustaría mucho incidir en la idea que quiero trasladar ahora el empleo decente

el empleo digno requiere no hacer tareas superiores a las de la categoría

requiere no verse obligado a realizar horas extras involuntarias que la mayoría de las veces no computan en ningún sitio a veces se pagan a veces no

requiere buenos tratos por parte de tus jefes requiere la ausencia de presiones para la vuelta al trabajo en situación de baja por accidente o enfermedad

y forma con copia de la nómina entre otras muchas cuestiones el trabajo digno requiere el derecho a conocer el plan de igualdad de la empresa para lo que tiene que estar hecho requiere conocer el plan de prevención de riesgos laborales requiere también

sin maniobras para a través del chantaje situar a veces a los compañeros contra aquel trabajador o trabajadora que está dispuesta a dar la cara como delegada sindical

todos estos derechos son vulnerados de manera sistemática en euskadi y no se pueden detectar solo con las necesarias campañas sobre los contratos de trabajo ni debemos caer ningún grupo en el infantilismo de creer que esas situaciones se resuelven diciéndole al trabajador que lo denuncie

no es fácil en muchas ocasiones directamente es imposible para las y los trabajadores saben lo que se juegan en un ámbito de absoluta jerarquía vertical como es la empresa nosotros pensamos que el gobierno tiene que bajar al barro del mundo laboral para poder detectar y demostrar estas situaciones si quiere revertirlas

apenas se puede percibir desde fuera del mismo se ve se vive y se sufre solo desde dentro

tiene que contar el gobierno de manera preferencial si quiere enfrentar esa realidad de la precariedad y esa lucha por el empleo de calidad la intención de elkarrekin podemos izquierda unida con nuestra iniciativa de hoy era empujar en esa dirección

de la clase trabajadora estamos satisfechos con un buen acuerdo creemos que empuja en esa dirección agradecemos al señor aiartza y al señor rico su buena disposición y el diálogo que hemos mantenido estos días para poder llegar a lo que yo creo que es un buen acuerdo quiero agradecer también a la señora

le faltaba un par de elementos que ellos consideraban importantes para estar también en este acuerdo

en la rueda nuestro grupo se va absolutamente satisfecho con una iniciativa que tiene unos contenidos que luego deberán ser cumplidos

empuja en esa dirección y que creemos y es el mensaje que aprovechamos para lanzar al gobierno y al resto de instituciones a las que se dirige la iniciativa que hay que bajar al barro

al barro del mundo del trabajo para garantizar el empleo decente

de este mismo año es decir apenas hace mes y medio los socios del grupo proponente de esta pnl trajeron a esta tribuna

en aquella ocasión se denominó sobre el compromiso de impulsar empleo de calidad

y lo han llamado defensa del trabajo decente pero el fondo es el mismo hasta el punto de que

el mismo texto copiado y pegado que presentó el veintidós de octubre

pero parece que estamos condenados a repetir el debate como quien repite curso a ver si ahora lo aprobamos como todos sabemos

por la organización internacional del trabajo como día mundial del trabajo decente para reivindicar que el trabajo esté justamente remunerado y se realice en condiciones de libertad

el principio de no discriminación antes de nada debo decir que por supuesto mi grupo mi partido yo mismo suscribimos total y radicalmente este principio

y cómo no va a ser así si ha sido el liberalismo el primer y principal defensor del ciudadano como sujeto de derechos y no los territorios por cierto

y en coherencia aprovecho la ocasión para condenar sin paliativos

que es el trabajo infantil y el trabajo forzoso u obligatorio situaciones que hoy

una vulneración terrible de los derechos humanos más fundamentales pero para llegar al fondo de la propuesta es necesario preguntarnos qué entendemos aquí hoy por trabajo precario es decir por trabajo no decente por una parte debemos entender que se trata de un trabajo no legal es decir de un trabajo que incumple la legislación laboral actual

sin cotizaciones a la seguridad social o con salarios en negro en todos estos casos lo que podemos y debemos hacer

porque la legalidad debe imperar estas situaciones de trabajo no legal se dan principalmente en las bolsas de economía sumergida

hoy para rescatar a todas las personas que se encuentran en esa situación y en esas bolsas otra cuestión distinta

al empleo temporal y con esto debemos de tener un poquito más de cuidado porque no todo el empleo temporal es precario hay personas que solo desean un empleo a tiempo parcial y hay empresas que solo necesitan trabajadores a tiempo parcial

es bueno y siempre cuando se respete la ley por supuesto como en todo

otra cosa distinta es que se aproveche para sustituir empleo fijo por contratos temporales encadenados práctica que ya está perseguida legalmente

de tipos de contratos con diferentes niveles de derechos con los que nuestra legislación laboral cuenta actualmente y que complica innecesariamente la gestión la contratación y el control la inspección la pregunta es qué podemos hacer al respecto

pero la realidad es que en euskadi tenemos dos inspecciones de trabajo una del estado para la seguridad social y otra del gobierno vasco para las relaciones laborales y la prevención de riesgos laborales

lo que es obviamente disfuncional pero hemos estado hablando con ellos y no creemos que haya un problema de escasez de recursos tampoco ellos lo creen aunque desde luego siempre es conveniente que se haga una evaluación objetiva e independiente de los recursos disponibles en función del objetivo

con el fin de optimizarlos y asegurar el cumplimiento de su misión que es

propuesta que también incluye algo que llevamos años defendiendo a nivel nacional

como forma de resolver el problema de la multitud de contratos en euskadi tenemos uno de los índices de temporalidad

en este pasado mes de noviembre en euskadi cincuenta y siete mil ochocientos catorce han sido temporales

han sido contratos temporales el noventa y dos coma cuarenta y cinco por ciento de los contratos firmados mientras que la media nacional

el contrato único acabaría de un plumazo con este problema solución

al igual que la mochila austriaca también propuesta por nuestro grupo respecto al punto tres de la propuesta

debemos decir que creemos que esto no aporta nada porque es exactamente lo que ya pone la ley vigente

por eso proponemos que se aplique de forma efectiva y rigurosa el artículo cincuenta y cuatro de la ley de prevención de riesgos laborales que establece la prohibición clarísima a la administración pública de contratar con empresas que hubieran sido sancionadas por infracción grave en materia de seguridad y salud laboral aplicando un sistema de bonus en la contratación de empresas con bajos índices de siniestralidad y de malus a las empresas con alto índices de siniestralidad en este punto nos preguntamos

todas las empresas contratadas por el gobierno vasco por ejemplo para las grandes obras de infraestructura cumplirían esta parte de la ley o nos veríamos obligados a parar inmediatamente todas las obras que están actualmente en ejecución

nadie está más de acuerdo que nosotros en que se cumpla la ley y también en este caso respecto al punto cuatro la propuesta inicial que luego no se ha trasladado a la

estamos en lo de siempre lo bueno es lo público y hay que potenciarlo y lo privado es malo y hay que reducirlo bueno nuestra opinión en menos dogmática es que algunos servicios

y muchas veces más barato respecto al punto cinco

de la propuesta que hice de poner en marcha un plan de trabajo garantizado por la administración para evitar los contratos precarios

estamos otra vez proponiendo la estatalización de la economía

y que les parece la solución a todos los problemas es una pena que en todas las dictaduras comunistas en las que se aplicó no funcionase y hoy todos estos países estén mirando rápidamente hacia una economía de mercado resumiendo sí por supuesto la defensa del trabajo digno legal y libre

sí a la mejora de la eficacia de la inspección de trabajo y sí al cumplimiento efectivo

la viceconsejera elena pérez señaló que el número de desempleados

por tanto el tercer mes consecutivo de bajada del paro pero aún hay

y no sabemos qué va a pasar con ellas seguramente por eso la viceconsejera pedía cautela y nosotras estamos muy de acuerdo con ella

pero señaló también las sesenta y dos mil quinientos cuarenta y uno contrataciones realizadas en la comunidad autónoma vasca de las cuales solo el siete coma cincuenta y seis

una temporalidad que se une a la tasa de empleo parcial que se sitúa en un treinta y siete coma cinco porcentaje que sube por encima del cincuenta por ciento en el caso de las mujeres para mí lo más reseñable de la comparecencia y lo digo en positivo y con total honestidad

expresó su preocupación por la persistencia de la precariedad

de forma estructural y que se ha agudizado como efecto de la actual crisis lo dijo ella y

o conversación que mantuvimos a propósito de la moción que nuestro grupo trajo a esta cámara sobre la necesidad de un pacto de país por el empleo de calidad

que luego llegó la pandemia y lo fastidió todo hablaban también de que la situación no era

hecho bien pero que teníamos asignaturas pendientes pero yo creo que

indican que tenemos algo más que una asignatura pendiente tenemos un problema estructural que es además persistente

a lo que se ha intentado vender de este gobierno o el anterior gobierno hasta ahora

ez transbertsalak lehen mailako estrategiak porque no tenemos un problema transversal tenemos una realidad tan real como la del desempleo y no requiere actuaciones trasversales sino acciones directas y medibles

en relación a la calidad del empleo quizá porque como en otras ocasiones si sabemos las consecuencias que tiene

la calidad en el empleo sigue siendo algo transversal en todo caso gaur ekimena proposatu duten taldeek akordio bat

baina egia da guretzako el acuerdo tiene elementos interesantes

es interesante que se recoja que se quieran mantener abiertas las vías de diálogo con el departamento de empleo a los agentes sociales institucionales y también los políticos

de este gobierno con lo cual lo ponemos en valor pero todavía nos falta saber en qué vamos a aportar o cómo vamos a poder aportar o cómo va a ser ese marco

podremos ir resolviendo esos elementos también nos parece que con respecto a esa estrategia de empleo dos mil treinta hay todavía muchos otros elementos de los que podríamos

nos han sacado un poco de este acuerdo que nos han alejado de este acuerdo batetik enplegu politika

de hablar en relación al empleo de calidad y el trabajo decente en base a la moción consecuencia de interpelación que planteó eh bildu

ya adoptó una serie de compromisos que hoy están plenamente vigentes pero no fue posible llegar a un acuerdo transaccional sin embargo yo creo que

en este así como los muchos planteamientos de fondo coincidentes que realizamos los grupos parlamentarios nos emplazaban a buscar

pienso que tenemos la gran mayoría de los grupos que nos sentamos aquí más puntos en común que puntos que nos separen y hoy finalmente hemos logrado ampliar el consenso en base a un buen acuerdo transaccional que yo creo que coincide con lo que los ciudadanos y las ciudadanas de euskadi están pidiendo

agradecer la actitud negociadora del señor hernández del grupo proponente podemos que ha propiciado que unos y otros reflejemos hoy en este compromisos concretos para conseguir ese objetivo común porque recordarán que yo ya en el pleno del cinco de noviembre decía que creo firmemente y lo vuelvo a decir creo firmemente que todos los que estamos sentados

compartimos el objetivo común de crear empleo y que en el ámbito del empleo el objetivo central tiene que ser crear

y ese objetivo es un objetivo que evidentemente compartimos los socialistas pero también es un reto que se ha propuesto y que ha asumido como propio este gobierno

y en el ámbito de sus competencias así se recoge tanto en el acuerdo de gobierno como en el programa de gobierno la vicelehendakari idoia mendia ha expresado en muchas ocasiones que es verdad que el gobierno no es el principal

de empleo pero los gobiernos también dice crean las condiciones para que las empresas generen empleos y los gobiernos también establecen el marco

sea de calidad nunca hemos ocultado que existe una hoja de ruta clara que ya ha marcado este gobierno y a la que se ha comprometido públicamente contamos con una guía que está bien definida en primer lugar con el programa de gobierno donde

doce compromisos y treinta y siete iniciativas concretas contamos también con el programa berpiztu que tiene como prioridad el empleo de calidad

y que cuenta con el resto de instituciones y también con la nueva estrategia de empleo dos mil treinta y sus futuros desarrollos sobre la base de lo que se ha venido construyendo en los últimos tiempos y contando con los agentes socioeconómicos

tendrá como objetivo introducir una visión de país que promueva la creación de empleo decente con salarios dignos con derechos laborales como eje transversal de las políticas públicas de todas las instituciones vascas pero ese compromiso

y tal y como hemos dicho en muchas ocasiones estamos absolutamente dispuestos a recibir aportaciones a esa hoja de ruta sin exigir a cambio contratos de adhesión

con la mesa de diálogo social que es el mejor instrumento de concertación de las políticas públicas a favor del empleo y donde todos los agentes tienen su silla y pueden aportar

pudimos ver en el pasado congreso de empleo celebrado los días veintiséis y veintisiete de noviembre en bilbao y se quiere hacer también de la mano de las reflexiones y aportaciones que los diferentes grupos parlamentarios puedan y quieran trasladar

esa hoja de ruta en el pleno del pasado trece de noviembre la vicelehendakari idoia mendia anunció una ronda de reuniones con todos los grupos que se está llevando a cabo

de contar también con las aportaciones de los distintos grupos políticos y con esta enmienda transaccional damos hoy un paso más que viene incidir en la voluntad sincera mostrada por la vicelehendakari idoia mendia de dar cauce a quien quiera aportar y así incluimos el compromiso de remitir a esta cámara la estrategia de empleo

a propuestas de resolución por parte de los grupos de la cámara y yo creo que

transaccional se recogen un buen número de materias para abordar en el diseño de esa estrategia para introducir una visión de país para un modelo de trabajo con derechos y garantías

objetivos y metas concretas en relación a la lucha contra la precariedad laboral en el punto tercero de la enmienda transaccional recogemos el compromiso

para seguir reduciendo los contratos fraudulentos incluyendo también nuevas acciones específicas

instamos a realizar una campaña específica en relación a los planes de igualdad de las empresas con plantillas de más de cincuenta personas

a potenciar los instrumentos de desarrollo coordinado de políticas de empleo a vincularlas con el fomento del empleo de calidad incluyendo el empleo público y la incorporación de cláusulas sociales que garanticen la calidad del empleo creo sinceramente que es un acuerdo transaccional muy completo

puede verse reflejada y lo que es más importante en el que gran parte de la ciudadanía vasca se verá reflejada que recoge compromisos muy concretos

porque redunda en beneficio de nuestra ciudadanía por todo ello les pido el apoyo a esta enmienda transaccional gracias eskerrik asko rico jauna

baina baita gainerakoei ere queremos volver a situar el paro por debajo del diez por ciento lo hemos dicho una y otra vez pero con la misma insistencia hemos dicho que no queremos cualquier empleo que queremos empleos dignos trabajos decentes sin exclusión con condiciones justas y adecuadas con protección y seguridad vital

un empleo que impulse y proteja la participación de la persona trabajadora que busque un reparto de riqueza justo y equitativo que reduzca el impacto

igualdad estabilidad formación y esta creo que es en la definición compartida como ya pudimos concluir en el pasado debate del cinco de noviembre como aquí se ha recordado

compromisos que el lehendakari y este gobierno han suscrito con la sociedad vasca y son compromisos que se van a cumplir esto señor hernández como dice usted

nosotros seguiremos trabajando para ello hemos vivido momentos complicados en el pasado con crisis y altas tasas de paro y como sociedad supimos responder

y quiero volver a aquel debate del cinco de noviembre moción consecuencia de interpelación de la señora kortajarena para rectificar alguna de mis palabras

dije que tenía una decepción procedimental por llamarla de una manera con su forma de actuar le dije eso argumentando que sobre esta cuestión había otra iniciativa que nos había traído con anterioridad la moción del señor hernández a través de una proposición no de ley sobre trabajo decente esta que hoy debatimos le dije que usted nos

de tratar esta cuestión con tranquilidad con tiempo pero que por otro lado había programado su moción para que entrase en el debate en pleno antes de la proposición no de ley del señor hernández y eso yo lo consideraba contradictorio le dije que podría

pero ello no quiere decir que únicamente esa fuese la manera adecuada de hacerlo

sentido al tratarla el cinco de noviembre señor hernández su iniciativa sí tiene sentido tratarla también hoy aquel era un debate que la señora kortajarena planteó centrado en las definiciones sobre

sobre las que podríamos concluir que estábamos esencialmente de acuerdo y sobre la metodología cuestión sobre la que quedó patente que nos separaba mucha distancia y sin embargo el debate que usted hoy nos trae señor hernández a mi juicio en cuestiones más concretas aunque de mucho calado la verdad es que el buen tono de aquel día como el de hoy me hizo reconsiderar mi planteamiento

con cierto detalle su justificación las dos ideas básicas enfrentarnos con la precariedad perseguir el fraude en términos de temporalidad y parcialidad

y económica como consecuencia de la crisis sanitaria evidentemente planteamientos con los que estamos de acuerdo si bien es cierto que nosotros tal vez los cargamos con algún epíteto menos pero son compartidos sin duda alguna por ello usted nos plantea enfrentarnos a esa realidad y nos presenta esta proposición no de ley una iniciativa en cinco puntos compromiso de reforzar la inspección de trabajo

con objetivos y metas cuantitativas cualitativas y evaluables con exigencia de cumplimiento de la normativa laboral y de los convenios colectivos

la verdad es que en cuanto leí por primera vez su iniciativa ya veía que estábamos cerca ese mismo día me puse a buscar cada una de las referencias que usted hacía en el programa de gobierno de esta legislatura compromiso de reforzar la inspección de trabajo y con objetivos y metas

iniciativas que desarrollan el compromiso nueve del programa de gobierno que se centra y se titula lucha contra el fraude laboral y refuerzo de la inspección de trabajo

es su prioridad la prioridad de este gobierno el empleo con exigencia de cumplimiento de la normativa laboral y de los convenios colectivos materializado en la iniciativa ocho del compromiso ciento cincuenta cuyo objetivo es gestionar los recursos públicos de forma responsable

al servicio de la responsabilidad social y del empleo de calidad persiguiendo una gestión pública transparente y responsable porque más allá de la mera modernización es preciso acometer una etapa que impulse el rediseño de la administración

potenciando el papel de los servicios públicos y centra usted el debate en la educación en la salud

es decir en las personas y además en las personas trabajando para personas todo el eje dos de nuestro programa de gobierno setenta y dos compromisos que se

precaria como se recoge en nuestros compromisos siete y diecisiete a partir de ese análisis casi aparecía como una secuencia lógica la necesidad de acordar un texto conjunto porque como decía al principio tenemos que enfocar el futuro

confrontación ante los retos fundamentalmente que en estos tiempos tan complicados estamos viviendo sin duda es un activo el poder colaborar dando soluciones en lo referido al empleo de calidad a todos nos corresponde hacer un esfuerzo mayor y con este acuerdo vamos por buen camino

el texto de la iniciativa original como también apuntaba el señor rico y aunque mantenemos su estructura en cinco puntos es evidente que es mucho más compacta

estas tres formaciones políticas el núcleo de la iniciativa la necesidad de seguir reforzando la inspección de trabajo el impulso de campañas específicas como las relacionadas

en las empresas y la potenciación de todos los instrumentos de que disponen las administraciones públicas para el desarrollo coordinado de políticas públicas que persigan el empleo de calidad

creo sinceramente que este acuerdo es una base sólida para reforzar el empleo de calidad necesitamos alianzas para responder a las necesidades de las personas

debemos sumar esfuerzos en la defensa de un trabajo decente y digno somos conscientes de las consecuencias del trabajo en precariedad

vulnerables historias rotas planes de futuro truncados realidades que exigen nuestro compromiso y nuestro acuerdo este grupo parlamentario nuestro grupo parlamentario el gobierno y el lehendakari tienen una agenda para conseguir este objetivo el empleo de calidad que es

de un modelo económico centrado en las personas una prioridad social en estos momentos de crisis e incertidumbre solo me queda reconocer a usted reconocerle a usted señor hernández y al señor rico en estos días

su actitud proactiva persiguiendo el acuerdo

por eso celebro este tipo de iniciativas en el parlamento la situación ya era mala en muchos casos antes de la pandemia y ahora mientras la sufrimos la situación

con la dignidad en el trabajo conforme al estado o calidad del mismo un trabajo decente en suma es aquel que permite a la persona desarrollar su vida

y que le deja crecer más allá de sus condiciones iniciales por supuesto podríamos detallar mucho más las condiciones necesarias para tener un trabajo decente pero dado el tiempo del que dispongo creo que queda claro por dónde vamos el señor jon hernández suele acertar con sus diagnósticos en lo referido a la situación de trabajadores y empresas sobre todo en las de euskadi han sido ya varias las iniciativas hablado de asuntos laborales y es justo decir que conoce con detalle y atina a la hora de ir a la esencia del problema nadie puede negar que hay precariedad nadie puede negar que hay condiciones laborales que no favorecen el desarrollo de las personas tampoco podemos negar que los convenios no siempre se cumplen

el asunto es que aunque podamos coincidir en muchos de los puntos como he dicho no todas las soluciones que ofrece me parecen acertadas

también coincidimos en donde solicita un programa cuantificable y con objetivos de cara a combatir la precariedad laboral y también coincidimos en lo relativo

con empresas que tengan sanciones por vulnerar derechos laborales pero esto es lo que ya recoge la ley en su base y por lo tanto

sin embargo no puedo aceptar la tendencia que tiene a solucionarlo todo con lo público pero esto no se ha recogido en la enmienda transaccional cosa que me agrada en vox creemos que los problemas denunciados o al menos el grueso de ellos

de la inspección que garantice que la ley se cumple que nadie pueda abusar de su posición y lo cierto es que si garantizamos este asunto la inspección

me quedan muchas cosas en el tintero como el asunto de la temporalidad que es otro de los ejes centrales de su propuesta pero como no tengo tiempo para debatirlo como se merece lo dejo en el tintero

reconozco que más allá del modelo de contrato que es un debate muy amplio y que tiene que ver con la naturaleza de nuestro sistema económico sin duda con una simplificación
de los modelos de contrato gran parte de la temporalidad se acabaría muchas gracias eskerrik asko martínez andrea

de los portavoces porque hoy no voy después de un acuerdo sobre todo no voy a insistir en la opinión que a nosotros nos puede

hasta la fecha o cuáles creemos que son las prioridades del gobierno vasco o la diferente visión que nosotros veamos

elementos y palabras que se recogen en los diferentes programas electorales programas de gobierno etcétera no voy a insistir en esa diferencia que tenemos una diferencia sobre lo que venía haciendo el gobierno vasco evidente pero no va a insistir desde luego hoy en ello cuando tenemos un acuerdo que yo creo que es bueno y que como decía marca una buena dirección

al departamento en concreto pero creo que al conjunto del gobierno vasco

sobre las que incide decía el señor rico que gran parte de la ciudadanía se va a ver reflejada en este acuerdo ojalá

la ciudadanía las trabajadoras los trabajadores en sus puestos de trabajo cuando están sufriendo esa realidad que evidentemente no la sufre todo el mundo pero sí como se ha dicho y creo que este también es un valor de la iniciativa reconoce también que es estructural cuando están en esa realidad normalmente este tipo de papeles

a veces le pilla lejos el convenio que les es de aplicación que muchas veces ni siquiera conocen a veces tienen dificultades simplemente para saber que tienen un convenio de aplicación

muy lejos pero sí ojalá ojalá porque si se camina

esta transacción pues desde luego pensamos que tendrá una repercusión en sentido positivo en la vida en las condiciones de trabajo

de este país porque el gobierno decía usted señor rico que los gobiernos crean el marco supongo que coincide usted conmigo en que no solo crean el marco y una de las cosas

es que además deben velar por que se garanticen

no solo crear el marco porque el trabajo no decente no se limita solo

al tipo de contratación y desde luego la idea que no puedo compartir de ninguna manera es la que traslada el señor

que no le sorprende cuando él dice que ha dicho que el trabajo no decente es el trabajo no legal

de trabajadoras y trabajadores que están sujetos incluso a condiciones legales a condiciones legales que sufren trabajo precario

al veinte por ciento de personas receptoras de la rgi no recuerdo los datos creo que era así

a una prestación de este tipo eso no puede ser de ninguna manera un trabajo decente y ese trabajo perfectamente puede estar dentro

además es un cúmulo de cosas que son diarias que son dinámicas que son cambiantes

de continuo no vale solo con una legislación por buena que sea y desde luego nosotros no compartimos que inspección de trabajo tenga las herramientas

siempre hemos puesto en valor el trabajo que hacen las y los inspectores de trabajo sabemos lo que hacen pero yo he visto las mesas de los inspectores de trabajo llenas de carpetas y muchas veces pues de denuncias y a veces los tiempos de respuesta

y además más allá del trabajo de denuncias más allá del trabajo de las campañas que se hacen es que hay muchísimo trabajo por hacer para llegar a sitios donde normalmente no se llega por lo tanto nosotros pensamos que sí que hacen falta más recursos

los recursos y a mí me parece una expresión muy importante los recursos suficientes para garantizar el empleo decente y para garantizar que se cumpla desde luego al mínimo la legalidad

del contrato único supongo que ya lo sabe señor gil vegas es verdad que tal vez haya exceso de tipos de contratos

para las que diferentes contratos pueden ser útiles un contrato único indefinido por ejemplo con una indemnización de mierda no va a ser mejor que un contrato temporal con una indemnización de mierda ya se lo aseguro no es esa la solución bueno besterik ez eskerrik asko a todos los portavoces por sus intervenciones

nada simplemente para dar la enhorabuena a los grupos firmantes de la enmienda transaccional

reconozco que tiene varias virtudes una de ellas es que ha conseguido

esta dialéctica décimonónica de clases de lucha de clases trabajadoras frente a capitalistas etcétera ha dicho el señor rico que este acuerdo esta enmienda

bueno eso es un problema que efectivamente yo creo que vamos a tener

y me temo que efectivamente la enmienda queda

no sé si llamarla floja suave es decir que no traslada realmente soluciones a los problemas de las personas que estén en situaciones precarias

tipo de precariedad sea la ilegalidad sino que es una de las formas y respecto al contrato único sí que querría que separáramos bien claro

es decir hoy lo que tenemos son contratos diferentes con derechos diferentes

simplemente muchas gracias eskerrik asko gil jauna

cuando nos animamos más y cuando salimos de los debates más preparados que traemos

estoy orgulloso de este acuerdo creo que es un buen acuerdo y ratifico las palabras creo que es un acuerdo que es bueno para la ciudadanía de euskadi y además yo creo que ese mensaje es importante porque lo contrario defenestrar la actividad de este parlamento es decir plantear que las enmiendas no llegan a la ciudadanía es tanto como plantear que las iniciativas que ustedes presentan como oposición tampoco llegan a esa ciudadanía es plantear que solo las medidas que toma el ejecutivo llegan a la ciudadanía

enlazarlo hay una mano tendida desde el ejecutivo para construir junto con el resto de los grupos de esta cámara la estrategia dos mil treinta y yo creo que eso es

es un acuerdo bueno para la ciudadanía y es un acuerdo que llegará a la ciudadanía a través de las medidas que luego se ejecuten directamente por el gobierno yo con respecto a algunas cosas de las que se han dicho al señor gil vegas igual le pego un susto pero yo eso de la lucha de clases tampoco lo veo tan mal tampoco

haciendo un relato de cómo se han hecho las conquistas sociales ha sido simplemente un relato histórico y fidedigno de cómo se han hecho esas conquistas sociales con el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de los sindicatos y me van a permitir y del partido socialista que lleva unos cuantos años trasladando a las instituciones precisamente todas esas conquistas sociales en los diferentes gobiernos yo

por sí mismo de hecho tener ese concepto nos impediría evolucionar cualquier trabajo legal que haya sido legal en un momento determinado pudiera haber sido considerado trabajo decente y esa definición

yo creo que efectivamente el trabajo legal se tiene que cumplir porque son las condiciones de legalidad que se dan pero evidentemente existe la posibilidad de que abordemos mejoras que tienen que ser abordadas por la propia evolución de los tiempos y esa es

con la equiparación de trabajo legal y trabajo decente además coincido con lo que planteaba el señor hernández

de trabajo decente también pasa por la derogación de determinadas reformas que se llevaron a cabo en la etapa del gobierno del partido popular y un apunte que sí le quiero hacer señor hernández

un mes antes yolanda díez decía los cambios a la reforma laboral tienen que hacerse

no se trata de correr y ya le anuncio le reitero lo que ha dicho la ministra portavoz del gobierno evidentemente eso no significa trasladar un veto

ni mucho menos ni a los empresarios ni a los sindicatos ni al propio gobierno con respecto a las cuestiones planteadas por

yo creo que sí tenemos que tener claramente el de dónde venimos para saber hacia dónde queremos ir y cómo podemos llegar y para

y hay un hecho que yo creo que es incontestable y es que antes de la pandemia los indicadores

y eso es un hecho que sí tenemos que tener en cuenta porque si queremos llegar a

de dónde venimos a partir de ahí nos decía que no ven pasos hombre yo creo que hay unos pasos muy claros le he dicho antes el programa berpiztu etcétera etcétera pero bueno hay una inversión clara

hay una apuesta clara por la innovación por la igualdad por el diálogo social y la concertación por la salud laboral por el refuerzo en la inspección laboral

la nueva estrategia de la que hemos hablado y la colaboración interinstitucional y yo creo que esos son pasos concretos establecidos ahora hay una hoja de ruta que durante en muchas ocasiones la vicelehendakari idoia mendia nos la ha planteado que comienza tras el programa berpiztu con esta estrategia dos mil treinta

que se abre a la incorporación a esta hoja de ruta que ha marcado el gobierno de las aportaciones que quieran hacer

me parece muy relevante que un gobierno que cuenta con mayoría absoluta en esta cámara decida traer a esta cámara para propuestas de resolución

esa estrategia yo creo que es un paso para que todos nos incorporemos a esta
en la que coincidimos por el trabajo decente nada más y muchas gracias eskerrik asko

para aclarar una cuestión que quería aclararle señora kortajarena referida a una idea la idea de proporcionalidad que yo

asignaturas pendientes como lo he hecho en más de una ocasión o como lo sigo haciendo o que yo reconozca que algunas de esas asignaturas pendientes sean anteriores a la pandemia como hizo la viceconsejera no significa o no implica necesariamente

global en el mundo del empleo ni implica necesariamente que yo haga una enmienda a la totalidad de la política de este gobierno una cosa no la otra aclararle que tampoco me molesta o me disgusta que usted utilice esa terminología usted la puede seguir utilizando es su derecho no sin ningún tipo de problema pero no me va

simplemente la considero una terminología o una imagen desproporcionada reconocer asignaturas

lo primero que significa y a mi juicio lo más valioso es determinar concretas áreas de mejora sobre las que hay que seguir actuando

buenos días hoy traemos a esta cámara el debate de la constitución como no puede ser de otra manera después del día seis de diciembre que celebramos el día de la constitución

un premio menor cuando lo que está en juego es la constitución española de la que emana esta institución y que da cobertura a todas las personas que aquí nos encontramos

la propia unidad de españa lo saben quienes están empeñados en acabar con lo que llaman el régimen del setenta y ocho lo saben quienes alentaron bombas asesinatos secuestros y extorsión para que jamás llegara a ser

a su nación para seguir en el poder llegar al momento actual no ha sido sencillo ha sido un camino plagado de escollos con enormes tensiones y extrema violencia

los nacionalismos radicales nunca quisieron una transición pacífica de ahí el apoyo expreso a asesinatos secuestros extorsiones y amenazas

condeno pero también me aprovecho de la situación en mi propio interés

vox llegamos con el firme propósito de defender nuestra constitución y la unidad de españa en aras de la igualdad entre los españoles sin complejos ni en cataluña

qué pretenden otros la respuesta es obvia en algunos casos sus intenciones son claras y públicas y turbias en otros

al tiempo que niega la palabra a la derecha quienes defendemos la unidad nacional somos enemigos y al enemigo

también está podemos gobernando sin haber renunciado a su objetivo de acabar

y hacer realidad una nación amalgama de naciones siendo muy comprensivos como confesó el señor iglesias con el vil terrorismo de la mafia de eta también tenemos a bildu con un señor al frente que hace veinte años acusaba al estado de la muerte de tres terroristas

llegó a decir con evidente enfado que los caídos son compañeros pues esos mismos socios

un partido que sin complejos rechaza nuestra constitución y anuncia el comienzo del camino hacia la república vasca

prácticos son sin duda y ahora juegan con miedo porque su socio el hombre del que ha hecho su mentira como seña de identidad ha hecho gala de su carencia de escrúpulos y ya ha contado que hay otros pactos posibles que hasta el gobierno vasco podría cambiar de titular

este pnv niega legitimidad al apoyo de la constitución en el país vasco por la alta abstención que aquí se registró prácticamente idéntica a la de las pasadas elecciones autonómicas que esta vez sí han dado como resultado un gobierno legítimo las palabras todo lo resisten la realidad no

la cuestión que le planteé al lehendakari respecto a la estabilidad institucional en aquel momento me afirmó que es fundamental garantizarla para poder dar estabilidad a familias y empresas y más en el contexto en que nos encontramos da estabilidad institucional decir que la constitución no sirve en el país vasco que el futuro de sus vascos pasa por aprobar

pues yo soy vasca también del nacionalismo vasco y lo que queda del terrorismo de eta no esperamos absolutamente nada sus fines están claros y lo están para todo el que quiera ver

hoy ofrecemos a sus representantes en este parlamento una oportunidad para certificar lo que me consta que algunos de sus compañeros sí que defienden

de dejar de lado la disputa partidaria y votar a favor de esta iniciativa garantizar la estabilidad de nuestra región la fuerza de nuestra constitución es fundamental para garantizar que las consecuencias del ejercicio de la violencia de eta sea cosa del pasado y ha de serlo para evitar que aquellos tiempos vuelvan

la mano para que ustedes digan sí a su compromiso con la constitución española en especial con esos dos artículos de los que reniegan las fuerzas políticas mayoritarias en este parlamento les tiendo la mano para que demuestren que son un dique de contención y que velan por los intereses de todos los españoles y que no creen que españa sea una rémora del pasado

dígannos quiénes son ustedes no les pedimos que compartan nuestros postulados solamente queremos saber si están o no con la constitución nos negamos a creer que en su partido todos mienten como pedro sánchez

no cabe cinismo en los principios básicos o están con la constitución o anuncien que la quieren reformar transparencia en la defensa de sus legítimos intereses

los objetivos reales de los partidos políticos que les piden el voto y dígannos a las claras quién es quién quiénes son ustedes qué es el pse qué quiere hoy podemos quiénes son los que se ponen de perfil

la constitución de la que insisto emana también este parlamento son ustedes los únicos que aún no han levantado sus cartas insisten en su juego oculto los vascos tenemos derecho a saber de manera oficial cuál es la postura respecto a los principios de nuestra constitución

sin defender los principios de los dos artículos que pido que se refrenden hoy en el pleno no es una cuestión de principio de autoridad la constitución es buena como dogma

pedimos que ustedes voten a favor de lo siguiente artículo uno punto dos de la constitución la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del estado el pueblo español en su conjunto por tanto es el sujeto de la soberanía nacional y de él emanan los poderes del estado artículo punto dos la constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española patria común e indivisible de todos los españoles

y la solidaridad entre todas ellas voy a centrarme en dos conceptos claves que se defienden en estos dos artículos la idea de soberanía nacional y la idea de solidaridad en lo referente a la idea de solidaridad pensando en la izquierda quiero hacer una reflexión breve sobre el alcance de su mención en el artículo punto dos la idea de soberanía nacional junto con la idea de solidaridad es el mayor argumento que podemos ofrecer a los españoles hace la fuerza y el reparto equitativo entre todos los españoles debe ser objetivo clave de los políticos ustedes hablan de igualdad pero saben que la igualdad de ley es mero papel mojado si no somos capaces de garantizar la igualdad material esto es la igualdad en recursos entre todos los españoles la crisis del covid diecinueve ve ha demostrado que juntos tenemos más herramientas más armas más capacidad

juntos podemos dar una cobertura mayor a los problemas globales los servicios se mejoran los recursos se multiplican por veinte en el caso de euskadi en conclusión hoy señores del partido socialista tendrían que decirnos si como dice la internacional trabajan para que nos agrupemos
o por el contrario ustedes también están por la separación muchas gracias eskerrik asko martínez andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz

gracias señora presidenta buenos días de nuevo señorías bien

esta es una iniciativa una proposición no de ley que lamentablemente será votada en contra y eso es una pena

siempre estará a favor de la constitución y además esta iniciativa me permite brevemente hablar de la mejor noticia que hemos tenido los vascos en nuestra historia junto con el estatuto

del setenta y nueve hacen un impresionante marco político democrático de desarrollo sin precedentes en nuestra tierra y en ese sentido pues está bien que la sigamos ponderando que sigamos

y teniéndola como referente además en una semana como esta semana de su cuarenta y dos aniversario la semana de la constitución

nosotros apoyamos los dos artículos que usted ha puesto en la proposición no de ley y los ciento sesenta y siete restantes de los ciento sesenta y nueve estos dos

las disposiciones transitorias las disposiciones finales no digamos nada las disposiciones adicionales esa disposición adicional

autogobierno y de nuestras libertades también de nuestros derechos de nuestra historia y en ese sentido

como gran conjunto como carta magna como elemento esencial

no importa la constitución se ha sobrepuesto

se sobrepone todos los días a los planteamientos nacionalistas está bien claro que los nacionalistas se van a resguardar en su voto en relación con algo que además a ellos mismos sí que les protege y les defiende pero en cualquier caso la constitución se sigue sobreponiendo a las negociaciones rupturistas a las cuestiones

la constitución está muy por encima de una proposición no de ley la carta magna tiene mucha fuerza que algunos infravaloran pero es un seguro de unión política es un seguro además de libertades y la tiene que cumplir el gobierno vasco lo diga la pnl

por eso yo creo que no va a votar hoy en contra de la proposición no de ley yo creo que no va a votar el lehendakari en contra de la proposición no de ley

de un patrimonio común la constitución es una seña de identidad que une al conjunto del estado al que pertenecemos españa

democráticas de libertades de derechos inimaginables hace cuarenta y tres años la constitución protagonista

clave para los derechos las libertades en españa en el país vasco momentos trascendentales en lo social en lo económico ahora también

y en nuestra vida europea la constitución de la concordia la constitución de europa la constitución de los estatutos de autonomía la constitución de la foralidad y de los derechos históricos la constitución de la derrota de eta y del terrorismo

la constitución de nuestras tradiciones también la constitución del euskera reformada en el año mil novecientos noventa y dos y en el año dos mil once por exigencias de nuestra pertenencia a la unión europea la primera para

para fijar el tope de déficit y las que tengan que ser y las que vengan por la vía

del acuerdo amplio del diálogo constructivo una constitución

de desplegar un autogobierno incomparablemente mejor que el de la mayor parte de los poderes regionales de las democracias

un autogobierno de lujo constitución que durará sin duda y que superará a iglesias

a los demás porque es una constitución potente porque es europea porque es propia qué importa que

ya lo han intentado durante cuarenta y dos años y ahí siguen en su desesperación histórica

no le parece tan mal se ha aprovechado bien de ella mantienen las distancias en el discurso

en sus postulados en sus garantías saben que la constitución del setenta y ocho nos desarrolla y que nos sirve

que seguir asumiendo como todos nos podemos imaginar y si hay que reformarla vuelvo a repetir en profundidad es posible tal vez sea necesario que se reforme apelando a ese consenso a esa mayoría suficiente a ese diálogo constructivo que tendrá que llegar desde luego desde el partido popular y ciudadanos por eso estamos en relación con esa cuestión abiertos a ese diálogo constructivo al consenso a

pero a poder avanzar también en su reforma si es necesario eso está ahí y desde luego ya para finalizar señora presidenta recordamos que el sí vasco a la constitución fue del setenta coma dos por ciento del voto válido

válido es decir tres veces más votos sí que no

eskerrik asko mahaiburu andrea paradógicamente la palabra unidad no tiene una acepción única y quizá desde ahí

el desacuerdo entre ustedes y nosotros ustedes se agarran a la primera acepción cada cosa completa

como una cualidad de lo que está unido no dividido y mire si siguen indagando sobre las múltiples acepciones descubrirá que hay otra que dice cualidad de las cosas entre cuyas partes hay acuerdo o coordinación mire como en la aprobación de los presupuestos generales del estado la diferencia entre ustedes y nosotros

es plural y a ustedes sin embargo solo les vale el suyo pero en realidad cuando ustedes ponderan ese artículo dos de la constitución no quieren hablar de unidad ustedes confunden unidad con uniformidad

la unidad ustedes quieren un país en el que solo quepa la manera de entender que nos quieren imponer su defensa de la constitución es tan impostada y tan falsa como sus propios principios democráticos ustedes solo apelan a ese artículo dos porque en el resto directamente no cabe su pensamiento bueno quizá

la bandera de españa el resto les da absolutamente igual o lo que es muchísimo peor son absolutamente incompatibles con sus convicciones

ustedes están militando activamente y constantemente contra la democracia contra la propia constitución contra el pluralismo político que instauró

que dicen defender contra el sistema autonómico y contra el carácter básico del individuo y sus derechos político la constitución tiene ciento sesenta y nueve artículos y varias disposiciones adicionales pero ustedes solo nombran un artículo en su iniciativa puestos a defenderla no la defiendan parcialmente

como hemos venido haciendo los socialistas desde el día que la creamos por ese artículo primero que habla de españa como un estado social y democrático de derecho

la justicia la igualdad o el pluralismo político saben ustedes qué es defender la constitución y defenderla a riesgo

es respetar la pluralidad y riqueza lingüística como patrimonio cultural artículo tres y no como un enemigo del castellano es defender la libertad sin discriminar a nadie por razón de nacimiento

defender la constitución no es construir muros contra las personas que vienen de otros lugares no es privar de una igualdad salarial a las mujeres por el mero hecho de serlo

no es privar a las mujeres de poder decidir sobre su propio cuerpo no es atentar a la libertad de querer a quien se desee sea del sexo que sea no es privar

y mucho menos es imponer su modelo de familia a toda costa

no es privar del derecho de culto a creyentes de otras religiones es respetar la libertad de enseñanza no es

es garantizar el derecho a un techo digno es respetar los tratados internacionales y no abogar por destruir el modelo europeo es defender

la disposición adicional primera que ustedes constantemente están atacando no es defender esa grande y libre

no es defender esa españa que machado definió como las dos españas en la que uno sus antepasados ideológicos se dedicaron a cercenar los derechos y libertades

y cosas bastante más graves que no voy a mencionar defender la constitución no es ponderar y reclamar como suyos a generales retirados que lo único que quieren es imponer el modelo que ustedes están defendiendo

se encuentran mis compañeros se encuentran esas otras personas se encuentran estos parlamentarios o aquellos parlamentarios todo aquel que no piensa como ustedes

tampoco es ser connivente diciendo que se puede estar de acuerdo o no

como ha hecho algún portavoz del partido popular eso sencillamente no es democracia eso no es libertad eso es un deseo inequívoco

algunos partidos llevamos más de media vida sufriendo eso

que ya hemos tenido bastante porque la constitución no es eso precisamente es la base sobre la que se construye el estado social y democrático que nos garantiza nuestra libertad pero sobre todo

la convivencia entre personas y territorios eso es lo que hay que defender y no únicamente esa parte que les gusta

deseos de transitar hacia algo que está muy muy muy lejos del espíritu democrático que además de hacernos iguales nos permite

me formulaba una pregunta me preguntaba si el partido socialista defiende la constitución y yo le respondo rotundamente sí

y tercero porque la defendemos desde su primer punto desde su primer artículo hasta el último cosa que ustedes no pueden decir desde luego que hoy

es quién a nosotros no nos falta no nos hace falta definirnos a ustedes tampoco porque ya les vamos conociendo de sobra eskerrik asko eskerrik asko

agradecer la intervención del señor barrio con el que coincido en todas y cada una de las palabras que ha emitido aquí

he visto como aquí hoy ha imitado perfectamente a odón elorza el otro día en el congreso por punto gracias por su ejercicio de caricaturizar a vox le pasaré el documento de las cien medidas de vox para que

tenemos que ir al punto de lo que realmente es por otro lado también decir que déjese de historias

los restos que está usted hablando son interpretaciones suyas interesantes evidentemente para su parroquia pero no para nosotros de defender la constitución sabe usted que nosotros sabemos mucho que nuestro presidente abascal sabe mucho

millónes de hijos de puta como acaba usted de decir aquí es algo muy barato que sabe que no es cierto

que ya podríamos hablar cuando se quiera pero creo que no es el momento porque a lo que yo he venido es a defender la constitución

le puedo decir cómo ha revivido la perniciosa guerra civil con la ley de memoria histórica cómo ha elegido rc y bildu como socios preferentes

iglesias vicepresidente y le ha dado el cni a un señor que en su programa la tuerca se congratulaba de querer dicho con sus propias palabras

han eliminado la posibilidad de las familias de educar a sus hijos

trabajan por eliminar cualquier atisbo de separación de poderes ya que nombrando a la señora dolores delgado fiscal general esa separación se vio tocada y por supuesto con su propuesta de la reforma del consejo del poder judicial

en la misma línea podemos hablar de su idea del ministerio de la verdad pero como he dicho no voy a seguir indagando en muchos más temas que podríamos sacar porque a lo que he venido

aunque por supuesto refrendamos desde el primero hasta el último no he venido tampoco a crispar

ustedes se posicionen que es lo que acaba usted de hacer y decir si apoyan o no la constitución

señora martínez tenga cuidado con el documento que me va a pasar a ver si se va a confundir y en vez de pasarme el programa electoral me va a pasar los principios fundamentales de régimen del movimiento

es de todos mis compañeros y compañeras y muy especialmente de aquellos que han estado en euskadi defendiendo

como le he dicho antes a riesgo de perder la vida y le puedo asegurar una cosa en la defensa de la constitución y la democracia en este país a odón elorza no le llega usted ni a la suela de los zapatos se lo puedo asegurar

a ninguno de todos y cada uno de los socialistas y de las socialistas que hemos aguantado aquí desde el primer día mire si ha habido un partido que ha defendido la constitución en euskadi

mire casualmente los únicos que hemos defendido la constitución en euskadi y que la defendimos en aquel referéndum fuimos algunos de aquellos señores y nosotros curiosamente los socialcomunistas que ustedes llaman ahora no no

cuando eso se debatió cuando eso se debatió en el congreso de los diputados

cinco se abstuvieron y otros ocho votaron a favor mire aquí defendieron la abstención sin ningún tipo de tapujos yo creo que es algo que no les debe avergonzar en cualquier caso deberían de ser de estar orgullosos

que han ganado unas elecciones en euskadi que tampoco está que tampoco está mal en cualquier caso a nosotros lecciones a nosotros
lecciones barrio jauna isiltasuna barrio jauna isiltasuna barrio jauna hirugarrena beste bat eta kalera zoaz de defensa de la constitución absolutamente

absolutamente ninguna en cualquier caso señora martínez

de esos militares retirados que tienen tanta afición por fusilar porque su compañera macarena olona lo reclamó como su gente

porque eso también dirá muchísimo de quiénes son ustedes y concretamente de quién es usted mire una única cuestión
creo que una de las cosas que más nos diferencia entre ustedes martínez andrea isiltasuna mesedez

es que nosotros hace muchísimos años que decidimos vivir sin rencor

que en el año setenta y ocho decidimos sentarnos con los herederos de los que nos fusilaban para pactar una constitución

nos da igual porque vivir sin rencor le puedo asegurar que no nos hace ni mejor ni peor persona

mucho más tranquilos desde luego nosotros nuestra conciencia la tenemos tremendamente tranquila independientemente de con quién acordemos unas cosas y otras porque cuando el partido socialista acuerda algo no lo acuerda

espero que a partir de ahora aprendan a vivir sin rencor aprendan a vivir para construir convivencia para construir futuro

en los que unos fusilaban a otros por pensar diferente eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu